eta urrekoei el parlamento vasco condena estos brutales asesinatos así como toda manifestación de violencia contra las mujeres y su entorno familiar especialmente contra los menores entendemos que la violencia machista es la expresión más grave de las desigualdades entre mujeres y hombres derivadas de relaciones de poder y de sometimiento de las mujeres

eta kontrola egiteko estas últimas semanas desde el gobierno han intentado en todo momento desvincular la negociación del cupo algo a hacer entre gobierno vasco y gobierno del estado y la negociación de los presupuestos generales del estado

incluso el propio portavoz del gobierno acabó relacionando en la rueda de prensa del veinticinco de abril ambas negociaciones recordando y cito

que el calendario está ahí presionando y este viernes acaba el plazo para presentar enmiendas a la totalidad

la realidad una vez más ha sido que algo tan importante para las arcas públicas de nuestras administraciones como la liquidación del cupo un desencuentro de nada menos que de diez años se ha reducido a un intercambio de cromos entre partidos a una negociación entre pnv y partido popular en despachos sin transparencia ninguna tú me apruebas los presupuestos a mí yo te los apruebo a ti y tan amigos

se supedita el cupo a las necesidades del gobierno de madrid de turno porque eso es lo que ha pasado algo que está definido en una ley la ley quinquenal del cupo una ley de obligado cumplimiento una ley que se aprueba en el congreso de los diputados durante diez años en entredicho porque a los sucesivos gobiernos de madrid les ha interesado son elocuentes para esto las palabras del propio alfonso alonso

y cito si no se ha hecho antes es porque hemos pasado años

el hecho de que ahora los gobiernos estén en situación de necesidad ayuda pero sobre todo la situación financiera del país era muy mala

más claro el agua los gobiernos de madrid no han tenido

intención de hacer correctamente las liquidaciones de los cupos desde el dos mil siete porque no les interesaba porque su situación económica era mala

porque sí hemos sido en definitiva el pagafantas de la cuadrilla ahora nos vendrán con las bondades del acuerdo de un acuerdo que da aire a un gobierno del pp acorralado por la corrupción a un gobierno del pp

a un gobierno del pp que va a seguir con sus políticas de siempre de recorte en derechos sociales de negación de la identidad de las naciones como cataluña o euskal herria de reformas en contra de los y las

reformas que señorías también son malas para los vascos y para las vascas no les quepa ninguna duda del gobierno del pp no sale nada bueno

para descontar de los cupos lo que indebidamente nos ha cobrado durante diez años es decir el estado ha negociado la devolución en cómodos plazos y sin soltar euro un acuerdo que da por bueno el esquema de subordinación ante el estado un acuerdo que da por bueno que el estado es quien tiene la sartén por el mango

cuándo y cómo ya se lo dije al señor lehendakari el baile lo inicia madrid y es madrid quien tiene la cartilla de bailes y elige la canción y así ha sido cuando y como ha querido y con la música que madrid ha querido y lo peor de todo es que al parecer al pnv le gusta este esquema de subordinación porque no lo pone en duda quizás quizás porque le da juego le da juego para vender acuerdos donde debiera haber aplicación directa de la ley

y le da juego para anunciar a bombo y platillo como dice un amigo mío que el sol sale por las mañanas akordio honek bukaera emango die hamar urteko desadostasunei

aldarrikatuz hoy unos y otros nos venderán su acuerdo hoy venderán estabilidad venderán confianza y todos esos espacios comunes

pero mañana mañana seguirá habiendo jóvenes con contratos por horas desempleados de más de cincuenta años que se ven fuera del mercado laboral por culpa

trabajadores pobres en el reino de la precariedad un sueldo mínimo interprofesional raquítico y miles de personas empobrecidas y sin trabajo mañana todas las políticas antisociales del partido popular tendrán un presupuesto que las respalde porque el partido nacionalista vasco así lo ha querido según ustedes por el bien de los vascos y las vascas señorías la cara b de su acuerdo

legebiltzar honek egin beharko lukeelako honen betetze maila kontrolatzeko decía que queríamos dejar clara desde aquí nuestra firme defensa del concierto

comunidad autónoma de euskadi tenga la potestad de generar y de administrar sus propios recursos un concierto económico que vemos indispensable para mantener de forma adecuada nuestro estado de bienestar sin embargo

usan una de nuestras herramientas más potentes como mera arma partidista en una evidente subasta de pescado una subasta de pescado

estructuralmente y ahogado por la corrupción y un partido nacionalista vasco sin escrúpulos que mira solo por sus intereses propios y por los de su trama

una subasta que en dos mil diecisiete comenzó cuando el partido nacionalista vasco ofrecía veinticinco millónes de euros para aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma de euskadi y que la misma señora gorospe nos lo recordaba en el pleno del pasado treinta de marzo cuando decía ofrecía al gobierno vasco para llegar a un pacto veinticinco millónes de euros

el pnv a cambio de dar finalmente veintinueve millónes de euros al partido popular al peor postor pactaron conjuntamente los presupuestos de este año

donde en madrid el partido nacionalista vasco hipoteca el futuro de la ciudadanía vasca al apuntalar y al legitimar la forma de gobernar del partido popular que ha hecho de la corrupción una práctica de gestión de lo público a cambio de qué pues por ejemplo a cambio del compromiso del gobierno vasco por la ratificación de acuerdos en materia de estabilidad presupuestaria hasta dos mil diecinueve y es que aún no tenemos muy claro cuál será el precio real

un acuerdo vinculado a las finanzas públicas se puede ver manchado

de los recortes sociales del partido popular y la validación por parte del partido nacionalista vasco tanto aquí como en madrid de una política económica neoliberal para satisfacer a las élites y a sus propios intereses el partido nacionalista vasco

el partido de las externalizaciones masivas o el partido del caso de miguel o del caso noticias se ha comportado como un mercenario del cupo

que nos hace renunciar a nuestros derechos y a la dignidad política y que lo hace legitimando la subalternidad de euskadi en cuanto a la negociación del cupo una negociación

está sujeta a favores políticos coyunturales que en nada beneficia a euskadi llevamos meses anunciando que este flirteo entre partido popular y el partido nacionalista vasco viene de lejos

y el inviable el pnv y el pp siempre han sabido remar conjuntamente a favor de las élites económicas y esto

mentía a toda la ciudadanía vasca señalando reiteradamente que un acuerdo con el partido popular era imposible pero no solo no era imposible sino que el gobierno vasco ha pasado del pie

al acelerador del tractor que le prestó mariano a aitor esteban ahora campan juntos tanto en el parlamento vasco como en el congreso de los diputados el apoyo del pnv a los presupuestos generales del estado es una derivada más de la imperante necesidad

y este apuntala y legitima un gobierno ahogado por la corrupción

como forma de gestión de lo público en contra de los intereses de una mayoría social a cambio de que el partido

y validar la política económica neoliberal de reducción del déficit a costa de nuestros derechos así el partido popular ha ofrecido como moneda de cambio

como derecho mala negociación es cuando tienes que mendigar algo que es tuyo por derecho y sí es un hito que decía el señor azpiazu desde luego pero un hito dentro del proceso de construcción

tal y como afirmaba el señor alonso si el roce hace el cariño esperemos que esa construcción de confianza no suponga que le cojan aun más cariño a las prácticas clientelares y corruptas del partido popular

ya han demostrado que han aprendido por ejemplo cuando lavaron la cara al señor maroto y al propio señor alfonso salvándolos de los tribunales decía

entre el gobierno central y el gobierno vasco tampoco está de más recordar que los últimos acuerdos presupuestarios del pnv en madrid

acabaron en sonados escándalos como puede ser el caso epsilon o hiriko

diecisiete millónes de euros públicos nos hubiera gustado que el partido nacionalista vasco hubiera planteado la negociación del cupo en términos de país y no en términos de partido ya que sin duda

para obligar al gobierno en minoría de rajoy a cumplir con la legalidad con el apoyo de todos los partidos vascos y nos hubiera gustado que se hubiera resuelto el problema enquistado del cupo sin contrapartidas y sin hipotecas sin que fuera moneda de cambio

le corresponde como parte de su estatuto de autonomía sin embargo el partido nacionalista vasco ha preferido hacerlo como si de una subasta de pescados se tratara

a toda la ciudadanía vasca la negociación del cupo no solamente se ha visto marcada por esa lógica de gestión de los intereses particulares del partido del gobierno sino que también se ha visto marcada por lógicas asociadas a otras negociaciones algunas relacionadas como puede ser el tren de alta velocidad

con subvencionar el precio de la electricidad para las empresas y satisfacer así a la patronal del metal todo este proceso de negociación ha coincidido además con el uno de mayo donde todo el movimiento sindical de euskadi ha reclamado

y en un periodo donde al partido nacionalista vasco se le ha llenado la boca hablando de gernika pero que en el mismo ochenta aniversario

no se le cae la cara de vergüenza al apoyar unos presupuestos que destinan cero euros en materia de memoria histórica

pues ni está ni se le espera eso sí a seguir pactando en diferido con la derecha en un lado y en otro de manera estructural

aunque nos dé pena que así sea creemos que la ciudadanía vasca debe saber que la negociación del cupo es el precio del apoyo del partido nacionalista vasco a los recortes a los desahucios a la ausencia del bienestar de la ciudadanía y a la corrupción y lo seguirá siendo a la vista de la tendencia marcada

decían ustedes ayer que todavía no había acuerdo respecto a los presupuestos generales del estado entre el pnv y el pp pero parafraseando a

anunciada para los derechos de toda la ciudadanía vasca un mercadeo de derechos entre un partido ahogado por la corrupción y que solo persigue los intereses de su particular oasis vasco tan alejado de la realidad y del día a día de una mayoría social de nuestro pueblo pero esto no es nuevo

el que llegaba a acuerdos con felipe gonzález el que apoyaba presupuestos del gobierno de zapatero que incluían recortes de un veinte por ciento en educación

entre otros para la patronal del metal en sus acuerdos en madrid porque digámoslo claro

no a la ciudadanía vasca sino a la patronal del metal o a las constructoras que se frotan las manos
con el tren de alta velocidad amaitzen joan bollain jauna eskerrik asko

la verdad es que después de oír las dos intervenciones creo que hemos pactado muy bien allí y aquí ahora me ha sorprendido

el tema hoy veníamos a discutir o valorar la propuesta de bildu y de podemos para llegar a un acuerdo con el estado negociando el cupo y parece que una vez que ha habido un acuerdo molesta

nos traían hoy aquí que se negociara con el estado que en fin hasta donde yo sé es el gobierno del partido popular el de mariano rajoy el que está allí gobernando si ustedes hasta antes de ayer o hasta ayer decían que era bueno y que había que hacerlo

porque tenían hasta la posibilidad de visto que lo que no les gustaba era el acuerdo si es que no les gusta el acuerdo haber hecho una transacción y traer aquí que debatamos que no nos gusta el acuerdo y que esta cámara vote en contra del acuerdo al que se ha llegado con el cupo

porque el acuerdo al que se ha llegado con el cupo es el que ustedes defendían cuando estaban en la diputación foral de gipuzkoa y nosotros en la de álava

por poner un ejemplo y ustedes han venido aquí hoy a decirnos que el parlamento apruebe una tabla negociadora relativa al cupo a negociar con el estado literal eso es el debate que tenemos hoy aquí yo pensaba que lo iban a retirar porque habiendo acuerdo

en el que casi todos los grupos de esta cámara estábamos de acuerdo antes pues no pensaba que les iba a sentar tan mal que hubiera acuerdo y lo sorprendente es que nos diga usted que claro se cumple la ley

y hay diferentes interpretaciones y usted sabe que en esta ley del cupo hace diez años se introdujeron unos artículos novedosos que nosotros ya dijimos que iban a dar lugar a problemas y surgieron los problemas

los que habían pactado esa ley del cupo fueron los primeros que no se pusieron de acuerdo en las primeras liquidaciones

y luego que hubo cambios en el gobierno vasco y cambios en el gobierno de españa y es un problema de interpretación desde aquí se interpretaba de una forma

a ustedes lo que por lo visto les molesta es el apoyo a los presupuestos porque es de lo que más han hablado ambos dos hoy aquí no han hablado

el acuerdo de los presupuestos les parece muy mal les parece muy mal porque se pacta con el partido popular yo a los dos

les voy a hacer solo una pregunta hoy a lo largo de este pleno va a haber varios puntos están seguros de que ninguno de sus dos grupos

están seguros por qué no se revisan en sus grupos si esto de pactar con el pp es tan malo a santo de qué están

llamando todos los días o qué pasa que si ustedes pactan con el partido popular es buenísimo

con quienes nos ponemos de acuerdo y como nos ponemos de acuerdo a ustedes qué les molesta del acuerdo presupuestario los tres mil quinientos millónes de la y hombre yo sé que ustedes son contrarios a la y

desde el principio les molesta nosotros estamos a favor

claro hasta el dos mil veintitrés que haya presupuestos en españa para que se pueda llevar a cabo esa ejecución en esos plazos con las inversiones previstas gobierne quien gobierne

o qué les molesta a ustedes que la tarifa eléctrica o no estábamos todos de acuerdo en que había que revisar la tarifa eléctrica porque le estaba restando competitividad a nuestras empresas y al empleo de las empresas vascas también les parece mal

les pasa como cuando pactamos aquí los presupuestos del gobierno vasco hace un mes que votaron casi todas

que se está en contra de un acuerdo que ustedes votarían que sí es complicado y complejo

ahora tiene su mérito ambos dos mucho mérito

criticar el acuerdo que ustedes defendían al que había que llegar me dirá usted que en fin que no tiene su cosa

traía una iniciativa a esta cámara para decirnos que llegáramos a ese acuerdo llegamos al acuerdo

en fin se lo podrían haber ahorrado retiraban el punto

no hacía falta hacer toda esta escenificación

nos dice que venderemos estabilidad y yo sí claro estabilidad financiera

para ayuntamientos diputaciones gobierno vasco y gobierno de españa

y estabilidad política y económica en el país vasco y en españa le parecerá mal pero mire va dando sus resultados y hoy tenemos datos de paro y de afiliación a la seguridad social pues que son record son record son muy buenos aquí en españa

pero en fin da sus frutos por lo menos a lo que a nosotros nos importa

que lo hemos dicho siempre y las inversiones que generan más empleo y dan más competitividad al país y a nuestras empresas

y yo señor de podemos señor bollain un gobierno basado en la corrupción hasta donde yo sé ni un solo caso de corrupción ha tenido el gobierno de mariano rajoy ni uno

y en otros se les defiende que es su caso que es su caso y les voy a decir una cosa lo que a mí me preocupa de este acuerdo en parte de su discurso porque el discurso de ambos es el mismo y ustedes dicen defender el concierto económico pero el discurso que han hecho aquí es que esto es un privilegio que se ha arrancado porque hay una negociación de presupuestos pero claro es que esto es lo que ustedes ambos dos han venido a decir aquí

que hacer estos acuerdos o plantearlos en época de presupuestos fuera tiene difícil venta porque todo el mundo al final lo vende como si fuera un privilegio y eso a mí me parece mal pero en cualquier caso yo les animo

si estaban de acuerdo con el acuerdo al que se ha llegado lo defiendan lo defiendan

lo digan pero lo que no se puede venir aquí a decir es que defendemos el concierto económico pero luego estamos en contra de los efectos del concierto económico y

criticarlos como si es una negociación un pasteleo y que por lo tanto da argumentos bueno pues usted pues sí pues digan pues muy bien pues ustedes sabrán cómo defienden el concierto económico aquí porque si piensan eso tendrán que decir que se suprima lo que no pueden pretender es venir a decirnos aquí que el concierto económico ustedes lo defienden mucho pero es insolidario con el resto de los españoles funciona

esa no es una defensa del concierto económico y yo lo siento mucho nosotros lo hemos defendido siempre con mayoría absoluta o en minoría y nos alegramos mucho de que por fin haya estabilidad financiera en el país vasco

un acuerdo sobre las liquidaciones de los cupos pasados y que tengamos espero que tengamos una nueva ley quinquenal del cupo cuando se pueda

y que la apoyen ustedes en el congreso de los diputados que tendrán la oportunidad de votarla y que desde luego resuelvan los problemas de interpretación que nos ha dado la última que aprobaron el señor rodríguez zapatero y el señor ibarretxe muchas gracias

bueno tenemos que debatir hoy una moción que curiosamente eh bildu registró hace casi tres meses en el mes de febrero

comprobaremos que todo lo que tenían para hoy ustedes lo habían tramitado por el procedimiento más rápido que es el de la moción pero que esas urgencias que a ustedes les entran pues las meten después en el congelador

de microondas y según sus necesidades mediáticas irlas sacando qué le vamos a hacer yo creo que ustedes se están equivocando en esa estrategia porque son el primer grupo de la oposición yo creo que sería más acertado que dedicaran sus escaños a

en este país pero en fin entremos un poco

supuestamente lo importante para su coalición era la participación del parlamento en la fijación de los criterios para acordar el cupo tan urgente que lo han dejado

el trabajo porque la iniciativa que se pretende debatir hoy ha caducado se lo ha dicho también el portavoz del partido popular y deberían haberla retirado no lo hacen alguna razón deben de tener para que no lo hayan hecho espero que no sea porque ustedes funcionen bajo la máxima esa que dice

usted me ha dicho así como que la realidad es tozuda tozuda la realidad y ustedes manteniendo algunas iniciativas que no tienen ningún sentido porque la parte dispositiva de su propuesta en la que someten a votación que por cierto ninguno de los dos grupos que han intervenido

en este apoyo ha dicho en qué consiste

especie como de apoyo que usted le ha dado para que la pudiera actualizar porque era una moción totalmente desactualizada y usted ayer le hizo el favor de meter una enmienda de adición ahí

absolutamente ya ningún sentido y por eso se ha extrañado también algún otro portavoz de que la pudieran ustedes mantener

y vamos a utilizar el mismo procedimiento exactamente igual que como se hacía cuando eusko alkartasuna formaba parte del gobierno vasco

con un gobierno entonces socialista en españa y exactamente igual

en españa y espero que ustedes no crean que entonces se subordinó

a montoro en el dos mil catorce en fin yo no sé qué hay de distinto en el proceso negociador de entonces y ahora y solo se me ocurre una diferencia es que ni eusko alkartasuna

y parece que cuando un partido no está en un acuerdo aunque sea institucional pues no les sirve

lo que pasa es que hemos pensado que como nosotros ya tenemos representantes en el congreso de los diputados y están en este momento precisamente en ese debate

preferimos hablar del concierto y del cupo y de la necesidad de lo que es la lealtad

cuestiones de las cuitas partidistas porque cada vez que nos olvidamos de ello cada vez que alguien habla de sacar tajada con nuestro autogobierno

para poder desarrollar nuestra responsabilidad y para poder ejercer también la solidaridad cada vez que hacemos esto cargamos las alforjas de quienes les gustaría podar nuestra capacidad de decidir sobre nuestras cosas

los socialistas en euskadi una vez más haremos el mismo discurso ahora que somos corresponsables del acuerdo sobre el cupo en el gobierno que el que hacíamos cuando eusko alkartasuna estaba en el gobierno

el mismo es decir que defendemos el diálogo el acuerdo y el pacto entre los vascos y con el resto de españa como la fórmula más eficaz que ha permitido el desarrollo de nuestro gobierno que se refleja en el estatuto y en el concierto económico

ejercer nuestra responsabilidad en materia de ingresos y nuestra solidaridad a la hora de compartir gastos y que haber llegado a esos acuerdos se traduce en prosperidad para nuestros ciudadanos en forma de servicios públicos como osakidetza escuela pública renta de garantía de ingresos instrumentos propios que gestionamos nosotros mismos por ello celebramos que los gobiernos de españa y euskadi hayan puesto fin a una década de discrepancias en esta materia

cinco años gobierne quien gobierne en uno u otro sitio porque este es su valor que esos acuerdos superen las coyunturas y necesidades de cada cual

no tenemos ninguna duda porque los cinco años anteriores demostró una nula voluntad no ya por un acuerdo en esto sino sobre ninguna otra materia que también puede haber una necesidad con un anterior gobierno socialista yo no se lo quito como argumento

como suelen utilizar en la hemeroteca aunque recordaría que cuando hubo que actualizar la ley quinquenal en el año dos mil once

y no hubo acuerdo y que tampoco el pnv entonces en la posición en euskadi lo consideró tan importante como ahora pero en fin si se trata de eso para todos tenemos como para quien intenta interpretar esta moción que debatimos hoy en diferido que pueda responder a otras cuestiones que no sean necesidades políticas o mediáticas que tengan los proponentes en el actual contexto informativo

porque es su obligación la de ambos desde la debida lealtad institucional y sobre

deben de beneficiarse de los acuerdos que alcanzamos en esas instituciones y en eso

pasa por intentar ningunear a los socialistas hacer pinza con podemos buscar de una forma u otra el acuerdo con el partido popular aunque eso sí luego van ustedes

de sus sedes yo estoy convencida de que a lo largo de la legislatura cambiarán y que irán dándose cuenta de que en esa estrategia elkarrekin podemos

y que son ustedes los que se están quedando fuera de foco a pesar de que son el primer grupo de la oposición ya les ocurrió echen la vista atrás

proponiendo reformas fiscales que facilitarán más ingresos e iniciativas sociales

o el derecho a la vivienda ustedes parece que siguen insistiendo en el mismo camino a nosotros lo que nos queda es invitarles a que se sumen al camino de los acuerdos a que pierdan el miedo al mismo

como a los socialistas no nos gusta el que hay en españa lo que sí nos pueden exigir cualquier ciudadano les guste más o menos un gobierno u otro es que cumplan con su obligación de hacer propuestas

a sus vidas y eso eso es lo que ha hecho el gobierno de euskadi el que hay con el gobierno de españa el que está y son muchas las cosas que vamos a tener que acordar por esta vía por la que ahora se presenta este acuerdo que es el de la legalidad y el de la voluntad política para hacerlo del otro debate del debate de los presupuestos generales

monográfico porque parece que no consiguen suficiente altavoz con sus dos representantes en el congreso es una necesidad

no compartimos eskerrik asko

tres meses eh bildu hace una interpelación al lehendakari pidiéndole que acordara con el gobierno del partido

para liquidar los cupos pendientes y avanzar en la ley quinquenal del cupo cómo es posible que ahora que lo acuerda pues

porque no lo han logrado ellos así el problema no es ni con quién se ha acordado ni los presupuestos ni el contenido

izan duzue gaur berdin hemen ese es el problema que tenían

en términos de erosión política a la imagen del

y del partido nacionalista vasco ese ha sido el objetivo eta hori da

el pnv de siempre esan duzu bollain

urkullu ejerce como presidente de una nación atzo bertan esandakoa

el pnv ha demostrado habilidad política como siempre el pnv ha demostrado habilidad política discreción y efectividad el pnv de siempre

discursos nos encontramos con el de su responsable en euskadi que está en madrid y dice el pnv ha mercadeado en términos de partido y no en términos de país lo que a mí me gustaría saber a qué país se refiere nagua alba porque a mí me da la impresión que con el acuerdo que el gobierno vasco ha logrado en relación con el cupo y el acuerdo que el partido nacionalista vasco ha logrado en otros

no es precisamente en términos de representante de euskadi

tendrían que aclarar si ustedes piensan en clave de españa o en clave de euskadi

esaten duzu el pnv no pone en duda este esquema de subordinación zenbat zenbat eta zenbat aldiz entzun izan duzu

alderdiaren interesen aurretik euskadiren interesak ipintzeko determinazio politikoa hay que superar la mera voluntad política que sirve para el discurso político y pasar a la determinación política independientemente de lo que a uno le puedan reprochar de lo que tengamos que anteponer los intereses de euskadi desde luego en todo momento a los propios intereses del partido asumiendo el riesgo en imagen y asumiendo que nosotros tengamos que pagar si es necesaria la factura política que dudo mucho

comprende entiende y aplaude el acuerdo pero asumiendo eso determinación política no solo voluntad eskerrik asko eskerrik asko gorospe

bueno una cosa hemos conseguido que partido popular partido socialista partido nacionalista vasco

la misma estrategia de defensa exactamente la misma señor damborenea que si esto es viejo de verdad es viejo es tan viejo que han bajado ustedes aquí

en todos los titulares de los periódicos esto es viejo hombre por favor díganme que no les interesaba hablar de ello hoy que es otra cuestión pero de viejo nada está de plena actualidad señor damborenea que es un problema de interpretación si ya se lo he dicho si el señor alfonso lo dijo

que no que ha sido porque el gobierno español no tenía dinero no es un problema de interpretación es que al gobierno español le ha venido estupendamente

de los vascos y las vascas esa ha sido la situación señor damborenea y usted lo sabe tan bien como yo y encima ahora lo va a devolver en cómodos plazos y es verdad encima no lo va a devolver

ni un euro ni un euro de madrid a euskadi ni un euro señor damborenea seguimos en las mismas bueno ya sí o sea ya que me diga usted que hemos venido a decir que el concierto es un privilegio y casi se me rasga aquí usted la camisa diciendo que cómo podemos decir usted me dice a mí que yo he dicho eso

del estado español señora cifuentes y otros presidentes de diferentes comunidades autónomas en algún momento

creo que no se lo tengo que decir privilegio y eso lo han dicho miembros de su partido miembros de su partido

jamás de los jamases ha dicho eso y usted lo sabe perfectamente señor damborenea nunca jamás porque no lo es

es que lamentablemente después de diez años de desacuerdos el acuerdo ha llegado porque el partido popular tenía una necesidad

para sacar los presupuestos del estado no ha llegado el acuerdo porque se ha dado un cumplimiento a la ley como la ley dicta porque durante diez años los gobiernos del estado se han pasado la ley han hecho pasa palabra con la ley porque no les interesaba porque era mucho más fácil tener financiación gratis eta amore como se dice en euskera

una necesidad puntual de sacar unos presupuestos del estado no por otra cosa esa es la realidad señor damborenea y no nos cuente otra

partido socialista bueno otra vez con el mismo isiltasuna mesedez hori da eskerrik asko presidente andrea

el mismo argumento que nuestra estrategia es bueno

que creemos oportuna para hacer política algunos presentamos mociones y otros se dedican a salir aquí a defender los acuerdos que hacen otros partidos en este caso pnv pp

algunos presentamos propuestas y otros se dedican a ser palmeros de los que gobiernan con ellos cada uno tiene su estrategia señora castelo

y tengo contacto con las personas que estuvieron aquí antes que yo

nada que ver con el bienestar de los vascos y nada que ver con la bilateralidad señora castelo absolutamente nada madrid ha dictado cuándo y madrid ha dictado cómo o es que de verdad me quieren hacer creer y lo he dicho en mi primera intervención que fue casualidad que fuera ayer

por qué tanto remilgo en hacerse fotos por qué tanto remilgo en hacerse fotos cuando se firman los acuerdos

parecía que con nocturnidad encima se hizo a la noche no se querían hacer fotos porque era una cosa discretita según palabras de algunas de las personas que estaba allí

que a los socialistas no les gusta el gobierno de españa sí sí si

por lo menos de los socialistas que están en madrid y dicen lo que dicen pero ustedes aquí

que ha conseguido un acuerdo porque su partido ha pactado los presupuestos del partido popular señora castelo eso es así

pues la sociedad apreció mucho los quehaceres del partido socialista y a los hechos me remito

eskerrik asko berriz ere señor damborenea lo que nos molesta es sumido en la corrupción lo que nos molesta señor damborenea es el primer partido imputado en la historia de la democracia lo que nos molesta señor damborenea es la operación taula el caso

caso imelsa caso acuamed lo que nos molesta señor damborenea es

imputados lo que nos molesta señor damborenea es

el señor rajoy fue llamado a declarar ante los tribunales

entre el pp y el pnv beneficia a euskadi yo repito que a quien beneficia es a los fines partidistas del pnv y a un partido popular ahogado por la corrupción beneficia a los intereses de la patronal del metal

las manos con el tren de alta velocidad dicen también que es un buen acuerdo para euskadi

décimos que este acuerdo lo único que hace es apoyar y validar al partido popular de los recortes y las reformas laborales que impulsan los despidos

ustedes el coste de este pacto en cinco años las rentas del trabajo han perdido cinco coma uno puntos novecientos noventa y dos coma ocho millónes de euros

se consolidan lo que en el ámbito económico se denomina como trabajos basuras beneficia este acuerdo a las trabajadoras de las residencias a las trabajadoras de los hoteles beneficia este acuerdo a las personas a las trabajadoras interinas en educación

beneficia este acuerdo a las personas perceptoras

contundentemente no señora castelo una pregunta para usted no es este

que tanto susana díaz como pedro sánchez decían que era un privilegio no es este el mismo cuponazo del que hablaba su partido hace apenas poco más de un año este tipo de declaraciones aparecen y desaparecen como el guadiana de sus barones aclárense primero antes de intentar dar lecciones a nadie y señora gorospe habilidad política toda

falta de escrúpulos y mercadeo de intereses también va a defender usted señora gorospe que los vascos somos mejores por algún motivo especial

unos presupuestos anti sociales del partido popular para que se haga negocio en nombre de los vascos y de las vascas ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda

y un estado plurinacional en el que la justicia social sea para todas las personas el cinismo señora gorospe es comparar un acuerdo de la oposición para rascar avances

con salvar la cara a un gobierno corrupto como el del partido popular en madrid eskerrik asko eskerrik asko

contratar a alguien defraudar a la seguridad social y pagarle en negro y aplaudirle allá usted y su partido

que alguien que no tiene derechos se adjudique una vivienda de protección oficial

usted siga defendiéndole a nosotros nos va a seguir pareciendo mal siempre

señora pinedo misma estrategia de defensa no queríamos hablar de esto

no sé quién no quiere hablar hoy del acuerdo del cupo

lo que hoy nos ha traído aquí es que acordemos llegar a un acuerdo con el gobierno de españa para

acordado usted ha venido a pedir que se acuerde ya está acordado por eso es viejo

no ha venido a hablar el cupo me dice la bilateralidad pues mire uno de los problemas de la bilateralidad que existe

es que si no te pones de acuerdo no se soluciona y llevamos diez años sin acuerdo precisamente por la bilateralidad y cuando yo porque yo sí lo planteé en su momento en la legislatura pasada

porque claro esto de la bilateralidad queda muy bien pero si al final no hay acuerdo cómo se soluciona

que es que no se pongan de acuerdo pues si no se llegan a poner de acuerdo nunca no se soluciona nunca un problema

bilateralidad pura y dura por eso hemos estado así diez años sin ponerse de acuerdo los que acordaron esa ley del cupo

no los demás y me dice usted problemas pues claro que hemos tenido problemas de dinero

yo no le voy a recordar cómo recogimos el gobierno de españa

sea no se lo voy a explicar las primeras decisiones el treinta de diciembre urgentes para poder pagar a los funcionarios y la prioridad

como las cosas han ido mejor porque se han hecho bien hay dinero para inversiones que estaban paradas pues se puedan retomar

no sé por qué a ustedes les molesta me dice usted que usted defiende

el cupo cualquiera que vincule el cupo o el concierto con el mercadeo está en contra del cupo y del concierto

así de claro el que lo critique o el que se ponga medallas en ambos casos y yo le he hecho a usted una pregunta usted está de acuerdo o está en contra del acuerdo

porque no nos lo ha dicho está de acuerdo o está en contra

es evidente que cuando hay un acuerdo ambas partes tienen que ceder pero yo no le he oído a usted decirnos si está bien o si está mal

y yo lo que le tengo que decir es que a mí me parece que está bien me parece que es lo que hemos defendido desde el país vasco antes todos ahora no sé

y nosotros seguimos defendiendo lo mismo y manteniendo lo mismo y nos parece bien que haya razonablemente una estabilidad financiera

los ejercicios anteriores y pueda haber una estabilidad financiera de cara a los próximos cinco años

en el partido socialista se me molestan mucho cuando hablo del señor zapatero

es que otro de los problemas que se creó fue con la ley de financiación autonómica de régimen común que aprobó el señor zapatero que también afectaba aquí y que luego aquí no se ponía de acuerdo

claro es que las cosas fueron como fueron

como creo que en política se está para solucionar problemas yo repito que me parece muy bien el acuerdo al que se ha llegado nos parece muy bueno y esperemos que a futuro se sigan resolviendo los problemas que quedan pendientes pero sobre todo lo que esperamos

tengan continuidad el año que viene porque si no tienen continuidad el año que viene y los siguientes pues no se podrán llevar a cabo o a efecto las inversiones y los acuerdos previstos nada más y muchas gracias

si no estaba de actualidad si usted sabe perfectamente que la propuesta

se han caído y otras se mantienen o las modifica o las cambia o dice

que el acuerdo la moción que usted nos traía ha perdido totalmente su sentido

a hablar a criticar el acuerdo y hablar el acuerdo presupuestario

por eso le hemos dicho que su propuesta es vieja por el contenido no por lo que usted quería venir a decir aquí

yo ya le he dicho que su estrategia que pueden ustedes tener la que quieran yo lo único que he dicho que a mí me parece que se equivocan

molesta lo sé y que suele hacer tener rumor en su bancada pero

tomar iniciativa o tener iniciativas cuando estamos en la oposición que puedan ser trasladadas a los ciudadanos

que ustedes se apuntan a rebufo estupendo si a nosotros no nos parece mal y a ustedes tampoco les debería parecer entrar en esa senda del acuerdo yo creo que ustedes tendrían que tener no tener miedo de salir de esa zona de confort en las que se han instalado desde hace mucho tiempo

de poder estar también en un gobierno y adoptar decisiones que tengan como consecuencia poder facilitar la vida de nuestros ciudadanos

y se lo diré tantas veces como vea que sea necesario

su forma o su estrategia y

podemos que me hablaba de que aquí lo que se ha hecho es pactar en diferido con la derecha

ustedes eso lo que les debió de motivar cuando teniendo la posibilidad de que hubiera un presidente que no fuera de la derecha ustedes decidieron votar no

frente a los intereses de los ciudadanos porque alguien se creyó algo que después las urnas no le dieron

lo que podemos suele utilizar en otras historias y luego claro viene aquí y se me desahoga

esto beneficia a las élites a la patronal etcétera lo que benefició a las élites y a la patronal seguramente fue aquella actitud que podemos tuvo

un año también les duele que se lo diga les molesta que se lo diga pero es que la verdad porque luego claro nos molesta el tema de

o llegar a un acuerdo con un partido concreto es apoyar una cuestión determinada yo a ustedes les preguntaría qué significa apoyar el setenta y cinco por ciento de las propuestas económicas que el partido popular ha realizado en este parlamento para aprobar los presupuestos del gobierno vasco

en pactar con el partido popular y en aprobar sus propuestas entonces no sé por qué critican de un lado para otro yo creo que el acuerdo es bueno si el procedimiento

o no que es lo que parece que a los proponentes de la moción original que no de la transaccional es lo que les pasa

que están trabajando con sus técnicos para el tema de llegar a un acuerdo en el tema del convenio que es en lo que se tienen que centrar que no les corresponde en este caso entrar a valorar el acuerdo que ha adoptado el gobierno vasco con el gobierno del estado que será este propio gobierno en fin que

del espectro total para finalizar señor bollain es usted tan previsible que me decía

que me haya hecho esa pregunta porque se lo he traído por escrito la respuesta y que se la voy a leer los socialistas vascos para que no le quede ninguna duda hemos defendido siempre la singularidad del concierto y que forma parte del mismo pacto que dio lugar al estatuto de gernika

el conjunto del partido socialista de españa ha reconocido esta singularidad con su inclusión en la declaración de granada que veo que usted desconoce
pero terminado este pleno yo le facilito un ejemplar eskerrik asko

atendiendo al acuerdo del cupo como condición previa para empezar a hablar la condición previa que el partido nacionalista vasco ponía y exigía al gobierno de españa que hablara con el gobierno de euskadi que una y mil veces señor damborenea que una y mil veces se le estaba pidiendo la voluntad para llegar a ese acuerdo bilateral y que llegaran a acordar

ezinezkoa da bata zein bestea están ustedes en dos contradicciones absolutas la bilateralidad exige firma acuerdo y firma de las dos partes sino

y si se quieren soluciones políticas a problemas políticos en todos los ámbitos de la vida tiene que ser a través del diálogo político y no a través del bloqueo son contradicciones que ustedes tienen condición previa liquidaciones pendientes del cupo y más cuestiones concreciones de las obras de la y vasca reducción de la factura eléctrica vasca por cierto bollain

fueron los representantes de los trabajadores quienes por favor pedían que se intermediara para que la factura eléctrica bajara para que se ganara competitividad y sus empleos pudieran ser estables estabilidad estabilidad inversión y empleo que esa es la prioridad del gobierno vasco

un paso una estación en el camino besterik ez gurea

eta zuek esaten duzue un acuerdo para beneficiar a las élites por los pasos a nivel quién pasa

lehen komentatzen izan dugu erdaraz en política tan importante como el argumento es la oportunidad del momento eta gainera

argumento y oportunidad del momento eta euskaraz esate bat dago

sobre cómo adaptar la economía vasca a los principios de la economía circular que nos vienen de la unión europea

mes y medio desde elkarrekin interpelamos al consejero de medio ambiente para que nos respondiera acerca de qué políticas y actuaciones pretendía llevar a cabo el gobierno

en breve desde la unión europea en materia de recogida selectiva reciclaje y compostaje y en concreto le formulamos una pregunta que no obtuvo respuesta y es cómo vamos a desarrollar la economía circular en euskadi si nos dedicamos a enterrar

la moción que presentamos hoy trata de dar respuesta a esa pregunta es una moción que propone medidas concretas y factibles para hacer que la economía vasca sea más sostenible y más competitiva es una moción que pretende impulsar otra forma de abordar la cuestión de los residuos urbanos en el ámbito competencial vasco y es en definitiva

porque cuando hablamos sobre economía y residuos tenemos que hablar de empleo si en euskadi se reciclaran todos los materiales reciclables se crearían

y si además la sustitución de los vertederos se hiciera por plantas de reciclaje y no por incineradoras se generarían otros ochocientos ochenta empleos

estos son datos procedentes de la comisión europea pero si hablamos de economía también tenemos que hablar sobre

entre ellas la mayoría de los metales unas materias primas de las que por desgracia euskadi carece qué es lo que nos impide crear riqueza y empleo

dejar de considerar los residuos como algo indeseable que hay que destruir a toda costa y pasar a percibirlos como materias primas valiosas y les voy a poner un ejemplo que todo el mundo podrá entender el del vidrio en los años ochenta

la única vía que les quedó para mejorar su competitividad fue la de ahorrar en materias primas y energía cómo

el vidrio de desecho y así fue como en nuestros pueblos y ciudades aparecieron los iglús no los pusieron los ayuntamientos

y hoy en día gipuzkoa por ejemplo es el territorio que más recicla de todo el estado en torno al ochenta por ciento de todo el vidrio que consume

personas que componen la plantilla de la fábrica de vidrala en llodio se imaginan que hoy en día algún iluminado hubiera decidido que en sus calles no se ponen los iglús

y es el siglo veintiuno por lo tanto en el caso de los residuos urbanos la economía circular pasa por reducir

exige postergar tanto el vertido como la incineración el vertido por lo que supone enterrar las materias primas y la incineración por lo que implica de destruirlas por eso en nuestra moción planteamos que se aplique una tasa dirigida gravar tanto el vertido como la incineración

diciendo que las incineradoras terminan con los vertederos nada más falso que esa afirmación por cada tres toneladas de residuos que se queman de la incineradora sale una tonelada de escorias que hay que llevar a un vertedero de nuevo

y ya puestos a desmontar fraudes y creencias erróneas volveré aclarar al igual que hice en mi anterior interpelación que la incineración también llamada eufemísticamente valorización energética no solo no produce energía sino que la destruye quemar una tonelada de papel como este

un árbol en esta hoja de papel basta con aplicar el primer principio de la termodinámica para darse cuenta del fraude y nos estamos quedando atrás

créanme que la puesta en marcha de la incineradora de zubieta en el caso de la incineración

por un lado vamos a tener que abrir nuevos vertederos como ya he explicado algo de lo que supuestamente nos íbamos a librar en bizkaia las escorias de zabalgarbi ya se están depositando en un antiguo vertedero de residuos industriales de zalla

les invito a que pasen por las inmediaciones y así sabrán a qué huele lo que sale de una incineradora se ha dicho también que la incineración es moderna y ecológica porque viene de alemania

lo dije en mi primera intervención sobre esta cuestión mientras en alemania reciclan el ochenta por ciento de los residuos y queman el veinte aquí vamos a quemar el ochenta y vamos a reciclar solo el veinte

todas las directrices europeas en materia de residuos el pasado mes de marzo el parlamento europeo aprobó un informe en el que se hace una serie de enmiendas a la directiva marco de residuos

el objetivo de recogida selectiva de residuos urbanos del sesenta y cinco al setenta por ciento

por eso también el pasado marzo preguntamos al consejero cómo piensa cumplir esos objetivos

porque si reciclamos dejamos a la incineradora sin residuos para quemar y parece difícil que eso se vaya a suceder porque cuando una incineradora como la de zubieta se diseña para quemar doscientos veinte mil toneladas de residuos y en toda gipuzkoa apenas se producen doscientos sesenta mil

o reciclaje o incineración o economía circular o incineración o riqueza y empleo o incineración por eso mismo es por lo que

porque el cumplimiento de la normativa europea nos va a exigir seguir trabajando a pie de calle

y de que separar los residuos en nuestros domicilios es aún mejor tanto para el medioambiente como para la economía del país y por eso me apena como ciudadano sensibilizado

en especial de unos años para aquí la tendencia que siguen algunos ayuntamientos y diputaciones es precisamente la contraria siguen considerando los residuos urbanos como un problema

sin caer en la cuenta de que cada kilo de basura que entra en una incineradora es un kilo de riqueza que destruimos mila esker eskerrik asko becerra

engloba la economía circular me parece simplificar demasiado este tema en cualquier caso yo he leído con mucho interés la interpelación que usted presentó en esta cámara y

nos decía nada más empezar la interpelación que la mayoría de los parlamentarios

nos suena nos interesa y compartimos todo lo que conlleva la economía circular y las oportunidades que nos da

y ha habido generaciones anteriores que hacían economía circular no la llamábamos economía circular pero sí lo hacíamos

lo hacíamos mucho más porque carecíamos de muchas cosas por lo tanto economía circular se ha hecho

y hemos tenido un periodo de tiempo donde nos ha llevado el consumo por otros caminos

eran erróneos pero

de reutilizar pero hay una premisa previa que es la prevención

y creo que en eso también hay que centrarse porque señorías podemos decir que hoy en la europa actual tenemos dos retos importantísimos

medioambiental cuidar el planeta porque en él nos va nuestra vida y el otro es el empleo y la economía circular responde a estos dos retos porque hasta ahora conocemos todos y es lo que más se ha hecho es la economía lineal que es extraer producir consumir y tirar y ahora

yo creo que se pone y va a tener muchísima fuerza y creo que en ello nos debemos empeñar en que se asiente la economía circular donde extraemos producimos consumimos y el residuo lo transformamos para que entre otra vez en la línea del consumo con lo cual efectivamente

y generamos una economía en la transformación del residuo y el empleo por lo tanto

actual generando empleo verde y otras oportunidades de negocio y crecimiento económico en esas estamos y qué necesitamos para

fundamentalmente un cambio importante en el comportamiento de los consumidores

sin los consumidores y los ciudadanos y los vecinos del entorno es incapaz de que la economía circular funcione

y además tienen que estar bien informados y no informarles a la contra y usted por ejemplo tanto en la interpelación como aquí ha utilizado la economía circular

porque además esa incineración también hace economía circular porque está quemando

por lo tanto si hacemos bien la separación que es a lo que debemos de tender y que esas son las políticas que debemos utilizar por lo tanto señor becerra

pues puede ser se podrá mejorar pero no es una cosa o la otra de momento no porque no tenemos la economía circular desarrollada en todo su potencial por lo tanto tenemos un periodo de tránsito y en ese periodo de tránsito nos hacen falta otras estrategias y esa

es decir no una cosa o la otra todo es necesario y hay que informar en este tránsito porque si no va a decir ya estamos un follón no me interesa nada no hago nada no aporto nada no colaboro y es muy importante es muy importante la colaboración de los consumidores

y es muy importante la colaboración de las administraciones porque mire

se legisla en los estados miembros se legisla en las comunidades autónomas donde se aplica

y se aplica con la colaboración de todos los agentes que participan por lo tanto yo creo que tenemos que ser muy conscientes

y a quién dirigimos y tener un mensaje muy claro al ciudadano porque si no no va a colaborar lo va a rechazar y usted no quiere eso yo tampoco por lo tanto como no queremos eso no vamos a hacer ese juego creo que eso es importante luego

sensibles a esta nueva realidad perfectamente comprometidas y perfectamente coordinadas y luego hay otros factores como son la innovación sin innovación somos incapaces de desarrollar técnicas de transformación de esos residuos y eso es imprescindible y por eso tienen que colaborar también agentes tan importantes

porque creo que es vital en este tema y por tanto las nuevas tecnologías en servicios en proceso en modelos de negocio esto requiere un cambio importante y por lo tanto tampoco es fácil de que se instale no se pasa a la economía circular de hoy a mañana

la unión europea también está diseñando una ruta de cómo ir enfocando esto por lo tanto no creo que aquí seamos más linces que nadie sabemos

y que luego cuaje y para que cuaje tenemos que hablar en positivo por favor que esto no es en contra de nada

creemos que es una oportunidad usted nos decía adaptar la economía vasca a la economía circular no lo que vamos a adaptar a la economía es

al mundo de la transformación al mundo del empleo también que nos va a generar no tenemos que adaptar toda la economía a la economía circular creo que

en las incineradoras se queman residuos pero de la fracción resto una vez reciclado

muchísimo esfuerzo y eso nos lo dice el informe que bruselas está haciendo de los estados miembros y nos lo dice en el informe que ha hecho sobre españa y nos dice nos describe principales retos que tenemos en españa mejorar la política del agua

la aplicación de la política medioambiental mejorar la gestión de residuos tenemos un déficit

para desarrollar economía circular y tenemos un trabajo importante que desarrollar también nos dice que debemos mejorar la fiscalidad medioambiental

perjudiciales para el medio ambiente dónde tenemos oportunidades pues utilizando el potencial de la naturaleza y su capital de gran valor el gran valor que nos ofrece la naturaleza es un potencial de oportunidad en españa reforzar

difundir las buenas prácticas utilizadas en zonas con escasez de agua y promover

y nos dice dónde somos excelentes en españa porque también tenemos puntos excelentes y mire hay bastantes aspectos pero hay uno que me ha gustado

capital verde dos mil doce pero qué está pasando en vitoria capital verde en el dos mil doce que por no tener una corporación firme y con objetivos claros

en las políticas que podía ser un referente en economía circular un referente porque tiene todos los mimbres tiene la sociedad más concienciada de toda europa técnicos fantásticos y medios y no se hace nada oiga

también un poquito de esto un poquito de esto que también somos responsables y tenemos capital para hacerlo y no lo hacemos

vende ciudad hay muchísimos turistas que se mueven especialmente en aquellos sitios donde se realizan políticas de este tipo

y lo tenemos paralizado bloqueado por lo tanto señor becerra

es algo más es un camino necesario para asegurar una sociedad sostenible y en ese camino necesario es el esfuerzo de las administraciones

y de los ciudadanos por tanto nosotros hemos presentado una enmienda a su iniciativa una enmienda que se basa

de españa tuvo en marzo donde hicieron un decálogo en ese tema porque hicieron un monográfico donde vinieron concejales de parís de

la ciudad probablemente donde primero se inició la economía circular en entornos

humano sensibilizado y capacidad para hacer estas iniciativas y se desarrollaron y explicaba perfectamente la concejala de parís cómo hacer bueno pues ahí se aprobó un decálogo que nos parece muy interesante

donde hacemos un hincapié de la importancia que tienen las entidades locales en la aplicación de la economía circular

como le decía antes aquí legislamos pero quien la aplica realmente y el éxito de esa aplicación es de cómo la entidad local desarrolle esa política

enfocarte podrá coordinarte porque también es bueno coordinación

evolucionen en una manera y otras en otra llevar un orden para que todo sea mucho más homogéneo en la práctica y en la manera de aplicar la economía circular a mí me parece un tema apasionante interesantísimo pero no para confrontar

ez luzatzeko hace exactamente un mes más o menos debatíamos en esta cámara sobre qué hacer con los restos de comida con los desperdicios de alimentos un debate que pudiendo haber dado algo más de si

de que el gobierno planteara dar pasos reales para evitar generar tanto desperdicio aunque sí que se concretó de verdad algo más para distribuir cómo distribuir lo que tiramos y cómo repartir lo que nos sobra hoy hablamos de economía circular que no de economía

en este círculo que nos cuesta oyendo las intervenciones de ahora mismo nos cuesta mucho cerrar

pero es tan urgente porque deberíamos estar tomando ya las medidas posibles para poder cumplir los plazos no solamente para cerrar el círculo sino para cumplir los plazos que se nos están echando encima la unión europea plantea unos plazos que parecen lejanos pero que deben ser el objetivo de las diferentes administraciones

es que para el año dos mil treinta el setenta por ciento de los residuos deberá ser reciclado

pero estamos en obligación de pasar de las palabras a los hechos hablamos hoy de economía circular una economía circular que nos obliga como mínimo a pensar si todos los pasos que estamos dando van en la dirección correcta

para encaminar y para dirigir todas las políticas buscando la eficiencia de los recursos pero de todos los recursos

pero no podemos ni debemos hablar de economía circular sin fijarnos en toda la cadena sin hablar de una forma de producción y de un consumo sostenible de un uso

en recursos duraderos fáciles de compartir utilizables recuperables reparables y reciclables no podemos hablar de economía circular si no hablamos de una producción integrada

una producción que debe ser sostenible y coherente unida a la demanda y no a los intereses de ciertos mercados con la liberalización de cuotas y de cupos de producción estamos consiguiendo justamente lo contrario estamos consiguiendo excedentes que luego se deben gestionar

que no sirven para cubrir la demanda pero sí que sirve para especular con ellos y desde luego para bajar los precios en origen tampoco podremos alcanzar la economía circular si no se dan pasos efectivos reales y valientes en todos los eslabones de esa cadena no solamente en la producción claro

prevenir reutilizar reciclar y compostar recuperar con otros fines como la valorización y finalmente eliminar este es el orden y no nos podemos desviar en función de los intereses ni saltarnos ninguno de los pasos debemos concienciar a la sociedad cierto lo acabo de oír aquí pero hay que

lideradas por el gobierno en este caso por el gobierno vasco desde luego en consonancia y en cooperación con las diputaciones y resto de administraciones locales

de la cantidad de buenas intenciones que contienen quiero entender que todas las personas que estamos en esta cámara compartimos los objetivos porque son comunes

objetivos por otra parte que se convierten en verdaderas obligaciones ante lo que

deberemos hacer todo lo posible por cumplir eso sí lo que verdaderamente diferencia de la moción principal del grupo podemos del resto de enmiendas es la concreción de las medidas a adoptar

es el punto cinco el punto cinco de la moción transada donde encontramos un paso importante al igual que necesario hay un principio que dice que quien contamina paga y ahora

por lo que tomar medidas efectivas tiene y debe dar resultados efectivos también gravando el vertido y la valorización energética instaremos a evitar la contaminación no podemos evitarlo

por lo que habrá que premiar a quien haga el esfuerzo por conseguir los objetivos marcados por lo que estaríamos de acuerdo en subvencionar a aquellas administraciones que consigan

y lograr los objetivos establecidos la unión europea como ya he dicho marca una jerarquía de residuos muy concreta con objetivos factibles y que desde luego aquí no estamos cumpliendo en eso posiblemente estemos todos de acuerdo

y medidas en positivo y de una forma coordinada desde europa se están dando cuenta ya que la segunda vida de los alimentos y de los productos

los productos se están acabando y es más necesario que nunca poner medidas vinculantes

desde aquí si estamos de acuerdo en que es un cambio es necesario eso es lo que puedo ver en las mociones estaremos también de acuerdo en que gestionar la producción el consumo y la gestión

sabemos que todos los pasos no se están implementando de la misma manera y sabemos también que no se está cumpliendo la normativa que viene de europa y el gobierno es responsable de esta inacción desde luego

de una vez por todas el liderazgo un liderazgo serio un liderazgo útil y un liderazgo que sirva para cumplir los objetivos porque los objetivos los diagnósticos las medidas las directivas los planes están desde luego absolutamente claros

pero tengo más preguntas quién tiene la responsabilidad de hacer cumplir todos los pasos es la sociedad quien tiene que asumir todo el peso se está haciendo todo lo posible para que la gestión de residuos esté de una vez por todas encaminada

si el objetivo es compartido por qué no hacemos la lectura de la situación una lectura exactamente igual

pero debemos dar un paso más allá y asumir cada cual su punto de responsabilidad como decía el gobierno vasco debe asumir el liderazgo que ha faltado hasta ahora y consolidar la función de las empresas

y la preparación para la reutilización el ejecutivo debe adoptar las medidas necesarias para promover el papel de estas empresas dedicadas a la economía social apostando por la contratación pública e incluir el paquete de la economía circular como no puede ser de otra manera para garantizar

en cuanto al papel de las diferentes administraciones pues debemos reconocer que no todas llevan la administración qué más quisiéramos que fueran todas a la misma velocidad y rápidas pero no no están dando pasos todas

y son muy concretos y eso sí las tasas de reciclaje son diferentes no solamente entre los herrialdes sino dentro del propio herrialde las diferencias son enormes aquí

y están dando pasos poco a poco ahí sí que pediríamos que los pasos fueran

para no encontrarnos luego con nadie que lo echa hacia atrás en eh bildu desde luego apostamos por residuos cero

como mejor fórmula para cumplir los objetivos europeos para los próximos años

de conseguir esa economía circular para conseguirlo pues vamos a instar a cumplir la jerarquía de residuos que nos marca europa de manera vinculante y que desde nuestro punto de vista no es hacer negocio con los residuos sino que es no producirlos es evitarlos en la medida de lo posible

vestir de verde la valorización energética debemos cerrar el círculo sí pero no vistiéndolo ni de valoración energética ni pintándolo de verde si tenemos que hablar de incinerar residuos pues lo llamamos así estamos hablando de quema residuos

estamos entrando en una gran contradicción deberemos producir residuos para que su incineración sea rentable para que esa planta dé beneficios sino tendremos que importar basura para poder pagarla de nada servirán los planes verdes porque a más reciclaje menos residuos

justo en el herrialde donde más esfuerzo se ha hecho por parte de la ciudadanía en cuanto a reciclaje a gestión de residuos a concienciación es donde van a tener que pagar por quemar sus residuos

ante el inminente arranque de las obras creo que la próxima semana y sin entrar en la gestión de la misma planta ni en el coste esta obra la verdad es que nace bajo una sombra de sospecha y yo creo que una sombra bastante alargada desde luego nombres como urbaser operación lezo ascasibar nombres propios con grandes fiascos a las espaldas no ayudan

confiemos en no encontrarnos ante una estafa a costa de los residuos y no solamente a costa de los residuos sino a costa de la salud de las personas no sería ni la primera ni una última vez

como los diferentes residuos de todos los tipos crean negocios crean intereses pero también crean dudas

pero los intereses económicos están por encima de los intereses de las personas yo pediría al gobierno que sea prudente no vale lamentarse después bukatzeko

nuestro apoyo como no puede ser de otra manera a la moción presentado por el grupo elkarrekin podemos

si queremos un cambio para promover la economía circular la batería de medidas está clara solo hace falta valentía y no tomar decisiones con cálculos electorales sino

para cumplir la normativa europea y que duren cuatro años eskerrik asko eskerrik asko lópez de

gracias presidenta y buenos días a todos no sé por qué no huimos ya en este parlamento de eufemismos si usted señor becerra y ustedes señores de bildu querían hablar de la incineradora hablemos de la incineradora pero aquí no vengan pretendiendo hablar de buenas intenciones

de la economía circular cuando realmente los dos partidos han hablado de lo que querían hablar si quieren hablarlo traigan el debate

al señor arriola en un pleno de control y se atrevía a decir que el señor arriola no le había contestado

otra cosa es que no le conteste lo que usted quiere y que no le guste la respuesta eso es otra cosa

hizo una moción perdón una interpelación pretendiendo hablar de algo que no se atrevía a decir y eso es lo que le planteó el señor arriola en su respuesta por tanto me gustaría que dejemos de engañar que intentemos obviar estas

que algunos además dentro de un propio partido dicen que pertenecen a esa rama más medioambientalista y se atrevan a traer los debates de los que verdaderamente quieren

para acabar hablando y poniendo en valor aquello que se hizo en gipuzkoa que parece que los guipuzcoanos no compartían viendo los resultados electorales y también decía el señor becerra algunos pretendemos soluciones rápidas y contundentes soluciones señor becerra soluciones necesarias a la coyuntura creada por la irresponsabilidad de algunos soluciones económicas a la irresponsabilidad de cheques

a empresas concretas de trece millónes de euros que se dieron para pagar las indemnizaciones a actitudes irresponsables de gobiernos en contra de lo acordado

anteriores y decía la señora lópez de arroyabe que compartimos objetivos en el discurso

por supuesto y es más creo que debiéramos de haber pactado esta iniciativa creo que hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan si hablamos de economía circular y creo además que no se ha querido pactar

proponente de la iniciativa pero como le apoya con gran entusiasmo al señor de podemos pues le diré que no se ha querido pactar porque yo entiendo que cuando alguien presenta una iniciativa y recibe enmiendas alternativas pues hombre pelos en la gatera

intentar negociar todos debemos de dejar lo que no puede ser es que todo parece que es contrario cuando no es verdad porque no hay más que ver las enmiendas de unos

y diré por qué pero antes de ello me sorprende que en esto de la economía circular no se haya hablado por parte del proponente ni de valorización energética ni de la promoción de la recogida selectiva y por qué no se hace señor becerra

pero no lo dicen abiertamente digan cuál es su modelo en vez de criticar uno digan cuál es el modelo alternativo porque para cambiar un modelo hay que tener un modelo que poner sobre ese

para que quede claro porque nosotros sí vamos a hablar claro los socialistas estamos a favor de la valorización energética como de transformar residuos en recursos energéticos que generen energía sin olvidar que en la jerarquía de residuos la última vía es el vertedero ustedes tendrán que dar respuesta a qué quieren hacer con los residuos

no quieren lo que se hacía antes no quieren lo que se propone ahora porque en el entretanto trece millónes de euros qué quieren hacer

a los ciudadanos dicho esto y sin dar más vueltas la iniciativa dice muchas cosas habla de europa

portavoz de bildu conviene decir que el parlamento europeo aprobó una sugerencia sobre varios instrumentos

para lograr una economía circular son sugerencias que deben adaptarse a lo realizado en cada territorio pero señores es que

se copia el modelo de gestión de los países más avanzados

tiene y de eso usted señor becerra sabe más que muchos de los que están en esta cámara a través de la valorización energética obtenemos energía contenida en los residuos que no se pueden reciclar

tanto por su impacto negativo sobre el medio como sobre la salud los países que más valorizan energéticamente son los que más reciclan y los que menos vierten

lo sabe habla de eso en su enmienda en su iniciativa hablamos de eso

no ha querido pactar al gobierno se le reconocen entre otras las competencias de la planificación autonómica y la potestad normativa

les corresponde a los territorios históricos y que no se les olvide aquí se pide al gobierno cosas que competen a las diputaciones que están cumpliendo con su labor

de la que también habla usted en su iniciativa y sobre la que no ha querido pactar y además hay muchas cosas incluidas en la moción

en materia de prevención y gestión de residuos aplicarán para conseguir el mejor resultado ambiental global la jerarquía de residuos por el siguiente orden de prioridad prevención preparación para la reutilización reciclado valorización y eliminación depósito en vertedero supongo que ustedes sabrán de dónde viene este texto

acepta de forma integral y que se compromete a cumplir los objetivos estratégicos de reducción de residuos tanto en su conjunto como en su tipología están fijados por ese plan sobre el que usted no ha querido pactar con los partidos que apoyan al gobierno

el parlamento europeo aprobó los informes de la comisión de medioambiente salud pública y seguridad alimentaria respecto al paquete legislativo destinados a potenciar la economía circular los cuatro informes aprobados por el pleno y que además se defenderán ante el consejo europeo para lograr trasladar los objetivos a la normativa

es que el término fiscalidad verde no solo se reduce a la determinación de gravámenes es que es mucho más que la determinación de gravámenes fiscalidad verde a podemos

ha retomado los trabajos técnicos que han de desarrollarse de la mano del departamento de hacienda del gobierno vasco así como las haciendas forales para establecer una política vasca de fiscalidad verde

porque el que contamina paga claro que paga por supuesto que paga y además así debe hacerlo asimismo creemos que merece la pena señalar que existen distintas líneas para favorecer la implantación y concienciación de la recogida selectiva

se nos dice que gipuzkoa es la provincia que más hizo que más hizo por imponer que poco hizo por escuchar y que menos hizo por la economía circular cuando gobernaban algunos por tanto creo que aquí todos debiéramos ver lo que hacemos por otra parte el gobierno vasco dispone del programa de compra y contratación pública verde del país vasco dos mil veinte

y ustedes señores de bildu y señores de podemos me quieren decir si no están de acuerdo

en hablar de fiscalidad verde y de poder pactar en el tema de la contratación de la jerarquía europea de las directrices es que no entiendo por qué no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo bueno sí lo entiendo

ustedes nos han traído esto desde el planteamiento del buenismo que les encanta en el gran titular que recogen a veces los medios de comunicación cuando

porque en el global estamos de acuerdo porque lo que tiene que ver con la economía circular estamos de acuerdo porque ustedes saben que todo pasa por hablar de fiscalidad verde del tema de la contratación por supuesto de cumplir y hacer cumplir las directivas europeas y por supuesto con tener en cuenta cuáles son las competencias de las diferentes instituciones pero cuando uno quiere pactar

y efectivamente señores de bildu señores de podemos ustedes hacen un tándem en casi todo y cuando tienen el acuerdo hecho es cuando llaman al resto

y que cuando se quiere llegar a un acuerdo hay que ser capaz de ceder y me gustaría que me explicara en qué punto no están de acuerdo

es lo mismo que he dicho yo lo mismo señor becerra y si no mire las dos enmiendas no ustedes no han hecho ni el esfuerzo de intentar redactarlo de otra manera porque ustedes quieren hablar de incineradora sí o incineradora no en eso

resumen el tema del reciclaje de los residuos del futuro de la política energéticade eso es de lo que quieren hablar por lo tanto como en alguna ocasión le he dicho

a otro parlamentario concretamente si quiere hablar de algo tráigalo a la tribuna

y nos posicionemos pero no intenten engañar porque este parlamento esta legislatura se ha cargado de eufemismos de los que creo que debiéramos huir eskerrik asko

pues en ese plan se recoge que existe un organismo de coordinación de residuos urbanos en el que participan

y que es el órgano principal de coordinación en la materia de gestión de esos residuos urbanos

prioriza claramente la prevención porque en todas las fases del ciclo productivo y de consumo usted coincidirá conmigo

una cantidad menor de residuos y se establece como objetivo que se reduzca esa generación en un diez por ciento también se habla de recoger y separar de seleccionar

entonces dígame en qué no estamos de acuerdo todo eso está recogido en un plan aprobado por el gobierno vasco cuando quien ahora comparte conmigo bancada era consejera

haya conceptos que usted no comparte y ahí estoy de acuerdo con la señora rojo y también con la señora

en esta iniciativa esconden en realidad otro debate otro debate que algunos hablamos de valorización energética y otros

ha empleado ya en varias ocasiones porque en la jerarquía de residuos que estable la unión europea y que a pies juntillas sigue el plan

habla de la valorización energética primero prevenir evidentemente separar reciclar y valorizar también energéticamente y por último el vertido que es el único que queda fuera del ciclo porque el ciclo hay que cerrarlo porque usted me dirá que yo sepa de momento

ni se pueden reciclar ni se pueden reutilizar qué hacemos con el resto lo vertemos seguimos abriendo vertederos pero no para las escorias como usted dice consecuencia de la incineración sino de los propios residuos que no podemos reutilizar

creo que ahí podría estar la diferencia que nos lleva a no llegar a un acuerdo el día de hoy

pero bueno tampoco íbamos a estar de acuerdo en casi todo y en el tema de la tasa

porque como hemos dicho antes dentro de la jerarquía de los residuos la valorización energética

porque hace que todos esos materiales que no los podemos ni reciclar ni reutilizar sí vuelvan al ciclo económico sin embargo el vertido los deja fuera porque no hacemos otra cosa y desechar para siempre unos materiales que no los podemos reutilizar entonces yo creo que valorizar y verter

grabados por igual sí estoy de acuerdo en que tenemos que gravar a quién contamina pero también debemos incentivar creo que en esta

de qué hacemos con los residuos creo que es muy importante la concienciación y la educación de la ciudadanía y evidentemente no todo tiene que ser penalizar por algo que entendemos que se hace mal sino que también si ponemos los medios adecuados para que la gente los pueda utilizar y pueda reciclar y pueda

también de alguna manera podríamos bonificar además en europa desde luego creo que bastante compartida la imposición quizás de un canon al vertido pero no puedo compartir con usted desde luego que se vaya a penalizar por igual algo que queda fuera de la jerarquía de residuos y de la propia economía circular con la valorización energética eta azkenik

ha dicho varias cosas en las que estoy completamente de acuerdo es evidente que todo lo que implica la economía circular no se puede recoger en una moción

también tiene razón en que en mi moción inicial le daba poca importancia a la prevención por eso tengo que agradecer la enmienda de eh bildu que ha aportado en ese sentido

de actitud es cierto pero también lo tiene que haber en las instituciones y ya lo he dicho claramente que no se puede seguir considerando los residuos como algo que hay que destruir a toda costa porque nos molesta

y la economía circular no incluye la incineración a diferencia de la jerarquía de residuos la economía circular no incluye la incineración usted presentó una enmienda a la totalidad bastante interesante difería

y mencionaba el acuerdo de sevilla en el acuerdo de sevilla entre las

no aparece la valorización energética aparece la prevención aparece la reutilización aparece el reciclaje el vertido cero y no aparece la valorización energética por eso me ha parecido en parte decepcionante aunque lo entiendo dado cuál es el contexto político en el que lo hace que al final haya llegado a una transacción con el gobierno porque

la que presentaban los partidos del gobierno evidentemente

solo quema la fracción resto aquí en euskadi no

pero aquí no ese es el problema ese es el problema aquí si se diseña una incineradora en gipuzkoa para que trate todas las basuras del territorio obviamente no está siendo diseñada

entonces el problema y veo otro problema en

y es que si me fijo en qué cosas le han quitado usted señora lópez de ocariz no solamente le han quitado la cuestión de las estrategias locales donde no aparecía la valorización energética le han quitado su punto cinco donde decía usted

tiene usted razón la economía circular nos ayuda a prevenir el cambio climático pero no a través de la incineración la incineradora de zabalgarbi es el segundo foco más importante de emisiones de gases de efecto invernadero de euskadi

eso significa que le estamos reduciendo o le estamos recortando las emisiones de gases de efecto invernadero a las acerías

y sin embargo estamos aumentando nuestras emisiones vía quemar unos residuos que podrían tener otro destino evidentemente no he podido pactar esta moción con el grupo del gobierno porque

economía circular señora rojo ni una sola vez esto en cuanto a la forma en cuanto al fondo hay dos cuestiones que sí son fundamentales

intenten confundir la jerarquía de residuos con la economía circular porque ya he dicho que la economía circular no incluye la valorización energética

y van a ir restringiendo cada vez más la valorización energética y sin embargo nosotros

entonces ese es un asunto de fondo que nos iba a diferenciar evidentemente

reciclar y compostar y si queda una fracción resto ahí sí podríamos pactar señora pero claro si ustedes están diseñando en el país incineradoras para quemarlo todo no es posible llegar a un acuerdo

si euskadi tuviera una fracción resto de un diez por ciento y quisiera incinerarlo

y dentro de poco plantearan otra para álava y entonces es imposible llegar a un acuerdo en ese sentido hay dos cosas que dice que son que son

energética la incineración no cierra el ciclo yo ya lo he dicho claramente no desaparecen los vertederos

y generamos tantísimos miles de toneladas de residuos

termina yo diciendo que claro que es importante concienciar pero

y ustedes decían vamos a boicotearlas echándolo todo junto en la misma bolsa eso no es concienciar a la ciudadanía y es muy importante que sean conscientes de que esta iniciativa no se ha hecho contra nadie pero tienen que saber que hay cosas que no son economía circular que no son reciclaje y que no son admisibles para

en la incineradora de gipuzkoa ni en la de bizkaia pero por decirle creo que la de gipuzkoa está diseñada

y creo que eso es así o sea que no lo sé pero esa es mi percepción de la situación

medioambientales y cómo se están aplicando tenemos un porcentaje marcado donde llegar con la economía circular pero

las acciones fijar las evaluaciones hay mucho trabajo por hacer

a aquello que nos va a venir marcado por lo tanto creo que lo hagamos ahora o que lo hagamos dentro de seis meses determinadas actuaciones

y la comunidad autónoma será la que tendrá que marcar en esas líneas por lo tanto yo

algunas cosas son precipitadas enfocarlas ahora porque no sabemos si realmente van a ir así en economía circular tenemos mucha teoría

muy poca por lo tanto vamos a dejar de hablar tanto y vamos a intentar que se vayan aplicando medidas y como le decía de manera coordinada coordinada

se lo he dicho antes eso es fundamental me decía

nosotros porque creo que es un trabajo muy interesante el que hizo

porque son los agentes que van a aplicar en definitiva estas políticas

entiendan comprendan y creen que es necesario y son los que nos van a explicar también dónde encuentran las dificultades y yo en la enmienda de transacción no he querido repetir toda la declaración y dicho que el gobierno aplique

la declaración completa sí que he marcado especialmente algunos puntos pero creo que está así recogido en la enmienda de transacción por lo tanto no me

nada comparto la declaración completa y además está recogido en la enmienda sí que he puesto especialmente algunos puntos que me parecen básicos como es la incorporación o el importante papel que tienen los gobiernos locales como le decía en las acciones de fomento y de desarrollo de una economía circular

y la colaboración con los vecinos pero es que también nos parece importantísimo

desarrollar y compartir unas prácticas entre ciudades en el marco de desarrollo de estrategias

y algo importantísimo involucrar a la comunidad científica es decir necesitamos innovación cómo transformar todos esos residuos que nos generan y cómo poder aplicarlos y cuanta más innovación incorporemos mejor esos recursos por lo tanto creo que compartimos toda la declaración de sevilla y esos puntos son los que nosotros nos ha parecido que los queríamos resaltar

por lo tanto como le decía señor becerra tenemos mucha legislación

está trabajando también la unión europea en un paquete legislativo de gestión de residuos tenemos el plan de acción

es bueno se tiene que desarrollar y también se está elaborando un manual de buenas prácticas en la economía circular con lo cual de alguna manera hay mucha legislación que va a llegar mucha directiva europea

marcarán la aplicación pero es bueno que trabajemos como le decía antes en concienciar a la sociedad y en concienciar en positivo y luego hablábamos hablaremos de impuestos o cómo incentivo aquel que realmente recicla y al que no

porque el ciudadano sí que nos cuestiona muchas veces yo reciclo y por qué pago el mismo impuesto de basuras

y que el ciudadano vaya asumiendo su responsabilidad

que mi vecino que le veo lo que echa en el contenedor hay cuestiones muy interesantes que debatir pero como le decía por favor en positivo

estamos de acuerdo que la economía circular tiene que pasar y tiene que ser práctica creo que usted y yo lo sabemos porque

muy cerca de la tierra y sabemos lo que cuesta y lo que es entonces en eso estaríamos de acuerdo que las administraciones locales tienen que hacer cosas de acuerdo absolutamente también no estoy de acuerdo tanto en que la green capital

por sus parques no tanto por sus residuos ni de la manera de gestionarlos a la señora rojo pues decirle que

en la negociación de las mociones no era mi papel pero de verdad que tampoco quería o sea porque saben ustedes que no se está cumpliendo con la normativa que la teoría la tenemos encima de la mesa pero ustedes en la medida que tienen la sartén por el mango no la están usando así que

haber entrado a pactarlo si de verdad nos estamos creyendo la economía circular

tan sencillo como eso yo lo veo muy sencillo pero por qué no es tan sencillo porque el cambio supone cosas y ahí

claro que cuesta el cambio siempre cuesta no es fácil es duro es mucho esfuerzo y les voy a dar un ejemplo que yo en mi propia casa lo tengo nosotros estamos pasando

eskerrik asko en nuestro ayuntamiento se está haciendo un impulso a la economía circular y en mi casa en mi propia casa en mi propia

bueno es tan sencillo como ponerlo en marcha y ser valientes y no ser electoralistas es verdad hablaba en la moción anterior el grupo nacionalista vasco también de empleo

la incineradora quema residuos sí crea empleo la economía circular desde la unión europea nos lo están diciendo habría una creación de empleo de cuatrocientos mil

empleos que de verdad sean sociales no queremos empleo como estamos viviendo ahora no puedo dejar pasar sin hablar

porque se ha demostrado que zabalgarbi no valoriza energéticamente los residuos lo explico rápido

para quemar basura qué es lo que hace tiene que quemar gas sí o sí gas más basura

vale y la eficiencia de la planta encima es de un cuarenta por ciento sin embargo las centrales de ciclo combinado de gas natural tiene una eficiencia del cincuenta y cinco por ciento esto significa que con el gas quemado en boroa por ejemplo

no se valoriza sino que se quema tan sencillo

voy acabando voy a acabar diciendo que la incineradora lo que nos da es miedo nos da miedo por qué porque tiene alrededor lo que decía antes unas sombras alargadas

está en un estado y viene la empresa una de ellas la más importante de un estado de corrupción sistemática y eso puede ser que también salpique

la economía circular hay que creérsela y voy a llevarlo a mi terreno y voy a hablar de ganadería por qué porque el futuro de las generaciones empieza en la tierra y empieza en el sistema primario y en el sector primario

economía es circular no es lineal creo que se nos está olvidando y creo que estamos hablando todo el rato

de sacar negocio de los residuos creámonos la economía circular

sino un futuro en el que creamos que nos comprometan y es verdad que nos cuesta trabajo pero yo creo que con el apoyo y por lo menos

entiendo que tendríamos posibilidades de hacer cosas eskerrik asko eskerrik asko

señor becerra si tanto le gustaba la enmienda de la señora lópez de ocariz está incluida íntegra que no esté escrito todo

comprenderá que está incluida íntegramente poner lo que se aprobó en sevilla es poner todo porque la señora lópez de ocariz lo que había hecho era un desglose destacando lo que ella consideraba más importante

pero está todo incluido por tanto no busque fantasmas donde no hay se ha unido a lo que la señora

nos resultaba interesante por otra parte me gustaría plantearles una cuestión y es si las normas de las que nos dotamos en los parlamentos están para cumplirlas sí me dice sin ninguna duda las directivas europeas presumimos en las tribunas de la obligatoriedad que tenemos de cumplirlas y las normas forales también

y cuando no nos gusta no las normas forales también están para cumplirlas y para no pretender a través de los juicios de los juzgados y de los pleitos pretender ganar algo contra las normas de las que nos dotamos en los parlamentos y eso es lo que algunos estáis pretendiendo en gipuzkoa y se habla de una forma

claro que tiene que llegar algo a los vertederos cómo están los vertederos están colmatados hay espacio o no lo hay

hace falta una solución a la irresponsabilidad generada por algunos o no

huyendo de rellenar papeles que todo lo sostienen para dar respuestas y soluciones reales a problemas concretos y esto de hablar así de una forma tan elegante de la economía circular pues yo les diría

es la economía circular del coche que sale del municipio lleno de basuras el maletero para haciendo una circunferencia llegar a otro y dejarlo allí o

eso es la economía circular que algunos ponen en marcha y defienden no la economía circular esta preciosa y maravillosa que llena textos y directivas en europa entonces no engañemos digamos qué políticas defendemos unos y qué políticas defendamos otros

coordinación en administraciones competentes aparece en la propuesta impulsar prevención hablamos del plan de prevención adoptar medidas necesarias relativas al plan de prevención y gestión de residuos incluido en la propuesta hablar

de la fiscalidad verde con la que entiendo que usted estará de acuerdo lo recoge la propuesta

implantar criterios de economía circular con las cláusulas de los procesos es que hay muchas cosas que usted sabe perfectamente que está de acuerdo con lo que proponemos

que es hacer oposición de la oposición es que la política no está para eso es que estamos aquí para otra cosa señor becerra y a la señora lópez de arroyabe

con semejante división que los ciudadanos nos han puesto si usted no quiere estar pues igual no tiene que participar en el debate porque aquí estamos para ponernos de acuerdo por no querer estar

por hacer consultas en los municipios que luego daba igual lo que dijeran

el tema de la incineradora de la que ustedes se empeñan en hablar que parece que el señor becerra dice que no que a eso no ha venido miedo

de las afecciones a la salud llevada esta misma legislatura a las juntas generales de gipuzkoa miedo es lo que se hace

manipulando la información que se le llega a los buzones de los ciudadanos eso es miedo y otra cosa que además del miedo hacen que me parece irresponsable alarmante

que ha pasado de eh bildu al partido socialista y en fin poquito tenemos que ver

intenta manipular y la gente es mucho más madura y más responsable de lo que ustedes creen mucho más

vistiéndola de europa de lo verde que no mire que no mire qué políticas de valorización energética hacen los países europeos que mire cuál es la fracción resto por ejemplo que tiene alemania y mira a ver si es lo que hacía gipuzkoa

y luego cuando ustedes se hacen adalides de la defensa de los ciudadanos

esos trece millónes de euros con foto con foto

de dónde salen de las arcas de los guipuzcoanos que son tan vascos como los alaveses y como los vizcaínos y son tan vascos los del psoe los de eh bildu los del pp los del pnv y podemos y ustedes solo defiendes a los suyos

y cuando no ganan algo democráticamente lo llevan a los juzgados sin darse cuenta que las arcas públicas están para otra cosa no están para eso

hoy a falta de camisetas pero también podía haber habido eskerrik asko

ekintzaren programazio ekintzen programazioak bideratzea hoy presentamos una iniciativa

consideramos que es una iniciativa interesante teniendo en cuenta que estamos al principio de la legislatura

teniendo en cuenta que la pasada legislatura hubo demasiados vaivenes o

a las planificaciones de las inversiones sanitarias estas estuvieron sujetas a las disponibilidades presupuestarias obviamente como

pero la situación presupuestaria al principio de la legislatura pasada conllevó a que las inversiones en la comunidad autónoma de euskadi las inversiones sanitarias

retraso respecto a las ejecuciones previstas y a los plazos previstos nosotros con esta iniciativa pretendemos subsanar esta situación y que ya desde el principio de la legislatura haya una planificación de las inversiones que se vayan a ejecutar a lo largo de la legislatura con un cronograma

acometer esas infraestructuras y con la financiación prevista

popular ha colaborado de forma muy activa y sobre todo también plasmando

planificación que finalmente va a realizar el gobierno se realizará no solo de acuerdo al programa de sino también de acuerdo a los presupuestos ya aprobados para este ejercicio como digo en los que el partido popular ha introducido

en algunos centros de salud consideramos

de las inversiones sanitarias para hacer un análisis y seguimiento de los recursos y también para potenciar la equidad en el acceso de la población

que existen posibles desequilibrios territoriales en los recursos sanitarios

de nuestro territorios por lo tanto cuando hablamos de planificación hablamos

ordenar acciones adoptar las estrategias necesarias para lograr los mejores resultados y una gestión eficiente de los recursos para ello es necesario hacer un diagnóstico una evaluación también de lo anteriormente

los objetivos estimar los recursos y programar las actividades que se van a realizar como decía previa

nosotros consideramos necesario que se haga una evaluación de las inversiones realizadas en este caso las inversiones

introducimos un primer punto que hablaba de que el gobierno vasco evalúe el conjunto de las inversiones realizadas en osakidetza a lo largo de la legislatura pasada en el marco de las líneas estratégicas y planes de acción de osakidetza dos mil trece dos mil dieciséis quiero decir que este

se ha recogido en su integridad en el punto uno de la transacción y por lo tanto estamos satisfechos en relación a las líneas

a seguir a lo largo de esta legislatura por parte del consejero y del departamento

y por parte del gobierno vasco el consejero el pasado veinticuatro de enero cuando explicó las líneas a seguir por parte de su departamento nos hablaba

y que uno de los aspectos claves precisamente para dicha modernización de nuestro sistema de salud es la renovación de equipamientos tecnologías e instalaciones entre los objetivos fijados para la presente legislatura en esta comparecencia el consejero nos hablaba de la puesta en marcha del hospital de urduliz

de la construcción del nuevo edificio de servicios generales del hospital universitario de álava

en el hospital de basurto finalización y entrada en servicio también del servicio de investigación sanitaria de biocruces y la construcción de seis nuevos centros de salud a largo de toda la legislatura como son los de amurrio campezo alde zaharra aiete donostia y zalla

nos decía el señor consejero en su comparecencia

que vamos a desarrollar esta legislatura porque algunas están iniciadas o bien porque estamos seguros de que simplemente con el presupuesto que traemos las podemos ejecutar pero también nos decía el señor consejero que ojalá se apruebe un presupuesto suficiente para poder hacer un cronograma mucho más extenso del que

del partido popular cuando enmendamos el presupuesto de sanidad ir más allá de las inversiones

dar un impulso a las inversiones que estaban en marcha y desde luego también poner encima de la mesa algunas de las inversiones que considerábamos necesarias y que no estaban previstas inicialmente en el presupuesto tengo que decir señor consejero lamento que no estén siguiendo este debate

y que esta vez sí ha hecho más caso el señor consejero y el gobierno vasco en su conjunto a las de inversión que ha presentado en materia de sanidad el partido popular a estos presupuestos siempre las hemos presentado pero en este caso también

mejorar la sanidad de los ciudadanos vascos teniendo en cuenta como digo las propuestas del partido popular así hemos

la inversión inicial prevista en el centro de salud de aiete hemos incrementado también en uno millón de euros la inversión inicialmente prevista en el hospital universitario de álava

y hemos previsto inversiones nuevas para

en este sentido y en relación a la planificación en la enmienda de transacción también hemos acordado un segundo punto en línea con lo que planteábamos en nuestra iniciativa

acorde como decía al principio de mi intervención con el programa de gobierno con los presupuestos aprobados en los que digo que se han mejorado sustancialmente con las aportaciones del partido popular y también con las necesidades que haya en los tres territorios o las necesidades que vayan surgiendo tengo

estamos al principio de la legislatura se han aprobado unos primeros presupuestos con la ayuda inestimable del partido popular que ha posibilitado que salgan adelante con esa abstención

se pueden acordar nuevas inversiones acelerar

que se están ejecutando o incluso abordar nuevas necesidades que podamos tener por lo tanto estamos satisfechos con el acuerdo alcanzado con el equipo de gobierno

constructiva y obviamente yo creo que la iniciativa

positiva yo espero que el resto de grupos eh bildu

esta iniciativa porque en líneas generales va en línea también con lo que

inicial y entiendo que también el grupo podemos al no tener una enmienda

de la iniciativa acordada espero atentamente las intervenciones para la fijación de la posición de los grupos

para lograr así un desarrollo total de la promoción de la salud y la prevención

ofrecer una alimentación saludable en los comedores de los centros hospitalarios basándonos en la priorización de productos ecológicos y modificando su modelo de gestión

además de poco nos va a servir acudir a un centro de atención primaria o a un hospital con reciente olor a pintura

si no tenemos derecho a recibir atención en la lengua materna de muchos y muchas

firmar sesenta contratos laborales diferentes o si después de una intervención de rodilla tengo que esperar seis horas en su nueva recién pintada y bonita puerta de urgencias para que un transporte sanitario me traslade a mi domicilio dirudienez gaurkoan baliabide materialen inguruko eztabaidan geratuko gara

podemos sacar en conclusión que la manera de planificar las diferentes inversiones que tiene este gobierno son absolutamente políticas totalmente lícitas como decíamos

este año más de cincuenta millónes de euros se puedan acordar consensuar o compartir con los diferentes grupos políticos y con otros agentes

en materia de inversión a los diferentes grupos políticos porque textualmente afirmó las inversiones aparte de mis propias intenciones

del conjunto de los grupos de esta cámara a día de hoy podemos afirmar que no dependen del conjunto de grupos de esta cámara sino del partido popular y del partido socialista porque las aportaciones que el resto hemos hecho a los presupuestos

por lo tanto como no compartimos la manera en la que se modifican en cuanto a ritmos y prioridades las diferentes previsiones en materia de inversiones vemos conveniente y necesario evaluar lo que se ha hecho en la legislatura pasada y planificar de una manera participativa

para sacar conclusiones analizar los márgenes de mejora aplicables en una posterior planificación y si se hace eso de manera compartida pues mejor que mejor bajo nuestro punto de vista por tanto está claro que no vamos a renunciar a los cuatro puntos de nuestra enmienda a la totalidad con su trasfondo y su importancia

las bondades de las inversiones ya realizadas sin ánimo de ir más allá horregatik guztiagatik gure osoko zuzenketa defendatuko dugu

otra vez y buenos días a todos el grupo socialista comparte la voluntad de rendición de cuentas permanentes en todos los ámbitos de la administración y servicios públicos

así como una previsión a medio plazo de las necesidades de la población

y porque en esa capacidad de planificación constatable no hemos conocido que haya habido nunca la necesidad de establecer un cronograma de edificios plazos y recursos

sobre servicios necesidades de salud a partir de lo cual es cuando se han establecido las necesidades de infraestructura no creo que estemos hablando de cosas tan diferentes los proponentes y nosotros por eso hemos llegado a un acuerdo estamos hablando de criterios diferentes a la hora de afrontarlos

luego los recursos que hacen falta lo sabe bien la señora garrido porque su partido hace un par de legislaturas enarboló la bandera por ejemplo de los tres hospitales en vitoria y fue

quien se tuvo que esforzar en convencerle y cambiar de opinión para acabar otra vez acordando eso es la reordenación de santiago como centro de semiagudos o crónicos la reubicación de servicios en txagorritxu y la apertura del nuevo edificio de consultas externas en ese mismo centro

pero todo ello dentro de esa profunda reorganización sanitaria esa transformación del sistema que fue la estructuración

la clave era estudiar las demandas y necesidades sanitarias

y la prevalencia de determinadas enfermedades y adaptar las infraestructuras y los equipamientos a los objetivos marcados los socialistas queremos que la reflexión siga siendo esa

de que a pesar del estrangulamiento de las arcas públicas en lo peor de la crisis

que como saben está condicionada por aspectos externos a la propia atención sanitaria

completando la red hospitalaria junto con otros servicios añadidos

atenciones a una población dispersa y también fue en ese mandato donde se previeron otras inversiones en infraestructuras imprescindibles en el futuro para la población de gipuzkoa en unos meses se espera la apertura del hospital de eibar que tanto costó que fuera aceptado y que atenderá a una población de más de noventa mil personas como centro de semiagudos o crónicos

o el arranque de una infraestructura como biocruces no ya para atender directamente a los pacientes sino porque creemos imprescindible la apuesta por la investigación biosanitaria

y euskadi no puede perder ese tren todo esto desde la integración de centros que se hizo en los noventa una vez transferidas las competencias hasta las nuevas infraestructuras que distintos consejeros han ido planificando forman parte de la inversión para garantizar el derecho a la salud porque nosotros no creemos que esto se trate de invertir en ladrillos sino de invertir en salud en la de la población en general a partir de la garantía de la salud particular de cada uno y esa inversión en salud se refleja en los hospitales y centros

todos los que participamos en la comisión de salud sabemos de qué hablamos salvo alguna excepción a nosotros no nos vienen los distintos colectivos

vienen a expresar la necesidad de determinadas atenciones que entienden no se les prestan

o como el otro día se acordó en la comisión servicios de podología para determinados pacientes

los que nos quedemos en el discurso de que no se pueden prever infraestructuras porque no sabemos la evolución económica ya he citado que en lo peor de la crisis cuando se nos negaban reformas fiscales que aliviaran las arcas públicas no se dejó de invertir como los ejemplos de gernika o urduliz

hay que saber coordinarlo con el de la ambición y que hasta la fecha no nos consta que antes haya sido necesario un cronograma para hacer posible la red pública

infraestructuras estas últimas que por cierto y para quienes aún sienten que les tiemblan las manos para firmar acuerdos todo esto todo fueron fruto de enmiendas presupuestarias que ahora tienen continuidad como compromiso de gobierno y ninguna de estas enmiendas socialistas ni una fue apoyada por quien hoy pide determinadas cosas en

ausente en la construcción de los servicios públicos en euskadi y en la pasada legislatura aunque estaba aquí en esta ocasión sí estaba y quería estar

este año no han tenido reparo en respaldar enmiendas del partido popular y no nos parece mal incluso podemos entenderlo como no tienen reparo en acordar con ellos cuestiones llamativas en aspectos sanitarios

junto con elkarrekin podemos precisamente el día en el que se cumplían cinco años del medicamentazo lo mismo que al día siguiente en el pleno en vísperas de uno de mayo respaldaban otras propuestas referidas a otros temas que ahora no vienen a cuento

las paredes de este parlamento y han vuelto a viejas prácticas acudir a la calle porque creen entender que le dan mayores réditos en los titulares donde pueden competir mano a mano con elkarrekin podemos siempre se unen como les he dicho anteriormente y se alejan un poco de las necesidades ciudadanas en la calle una cosa y aquí otra pero los socialistas no renunciamos a la calle

reclamamos que las condiciones de quien presta nuestros servicios públicos sean dignas y que se materialicen en acuerdos

que los trabajadores y trabajadoras sean proactivos en aportar propuestas de mejora pero luego en lo que nos compete en lo que es nuestra responsabilidad aquí dentro como parlamentarios y parlamentarias

soluciones y desde nuestro punto de vista las soluciones de infraestructuras y equipamientos pasan por ir determinando previamente las necesidades tenemos un plan de salud

pero tenía una mirada larga que culmina en esta presente dos mil veinte esa es la práctica histórica la de los planes de salud a largo plazo

a lo que quieren y requieren los ciudadanos nos parece bien esa evaluación permanente esa rendición de cuentas y nos parece que la planificación es la garantía de la prestación de los servicios pero los edificios que se prevean no van a ser el medidor de la calidad del servicio que los ciudadanos sigan pensando que tienen un sistema público de calidad que hay que preservar por encima de cualquier intento liquidacionista como el que hemos visto en otros lugares

pero sobre todo necesitamos una estrategia sociosanitaria eficiente con atención de profesionales en domicilios y con una implicación activa de la ciudadanía en su salud por lo tanto creemos que la enmienda que hemos acordado con la señora garrido

lo que ella planteaba inicialmente en la filosofía de la iniciativa original por lo tanto agradecemos

hecho para poder firmar este acuerdo nada más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria otalora andrea zurea da hitza

que por otra parte creo que compartimos todos los grupos que estamos representados en este parlamento

en equipamientos y tecnologías y en sistemas de información son clave para mejorar la calidad del servicio sanitario para ofrecer respuesta a las prestaciones asistenciales existentes

por otra parte tampoco creo que puede ser cuestionable por nadie que es necesario el diseño adecuado de una planificación responsable de las infraestructuras y equipamientos que se han de ejecutar

así como de la propia evaluación de las inversiones que se ha realizado en lo que no coincidimos es en la necesidad de tener que elaborar un nuevo plan de infraestructuras y equipamientos que esta planificación creemos que ya existe y se ha procedido a su presentación y exposición en detalle a través de la presentación del programa de gobierno para esta legislatura que llevó a cabo el propio lehendakari el pasado mes de febrero en dicho documento se recogen los compromisos adquiridos por el gobierno con la sociedad vasca

se concretan las diferentes iniciativas destinadas a promover la mejora y modernización del sistema sanitario a la gestión eficiente de los recursos sanitarios e innovación en métodos de gestión y a potenciar la investigación y la innovación sanitaria para ello se recogen compromisos y se detallan iniciativas concretas

este programa de gobierno contempla una serie de compromisos e iniciativas

garantizar infraestructuras sanitarias adecuadas a las necesidades de los pacientes para ello se recogen actuaciones concretas que no voy a detallar puesto que ya las ha expuesto en su intervención de forma detallada la señora garrido anteriormente y ha hecho también mención a ellas anteriormente la señora blanco

optimizando métodos y recursos para lo cual entre otras iniciativas se recoge por ejemplo la de evaluar sistemáticamente las nuevas tecnologías para mantener permanentemente actualizado

muchas de estas actuaciones concretas además fueron ya expuestas por el consejero de salud en el mes de enero cuando presentó las líneas generales del departamento

proyecto que ya es una realidad y una de las líneas fundamentales de dicho departamento

es precisamente la de la sostenibilidad y modernización del sistema sanitario siendo un aspecto clave el mantenimiento y renovación de equipamientos tecnología e infraestructuras en osakidetza y para ello en el presupuesto para este ejercicio dos mil diecisiete la partida para inversiones e infraestructuras y tecnologías de osakidetza

un incremento bastante significativo respecto al presupuesto del ejercicio anterior y es precisamente en el presupuesto

en base como no podía ser de otra manera a los compromisos adquiridos compromisos que como he dicho anteriormente están perfectamente detallados en el programa de gobierno para la presente legislatura por supuesto teniendo en cuenta las necesidades del sistema sanitario inversiones en infraestructuras y equipamientos con criterios de sostenibilidad y equilibrio territorial que permitan priorizar adecuadamente los recursos además de garantizar que el sistema de salud

a las necesidades de las personas ya que en definitiva son el centro de nuestro sistema sanitario y por tanto todas las actuaciones que se desarrollen en dicho sistema tienen como objetivo fundamental y prioritario su bienestar por ello y dado que uno de los aspectos clave para la modernización de nuestro sistema de salud

así como disponer de instalaciones accesibles y adecuadas en el presupuesto del departamento de salud para cada ejercicio se recogen convenientemente periodificadas y territorializadas

porque no podemos obviar que los presupuestos deben de estar en consonancia con las prioridades que se hayan identificado y deben de sacar el máximo partido a los recursos disponibles es por tanto en el presupuesto donde se han de recoger específicamente las actuaciones a abordar a lo largo del correspondiente ejercicio

se distribuye por tanto el dinero disponible de manera equilibrada y adecuada a sus necesidades entre los territorios de forma sostenible

este gobierno desde la responsabilidad y atendiendo a los recursos disponibles planifica las inversiones que precisa el sistema vasco de salud en su camino de mantenerse como un sistema de salud de referencia

siendo así coincidiendo en esto con el grupo popular hemos acordado el grupo socialista y el grupo nacionalista vasco una enmienda de transacción por la que instamos al gobierno a elaborar y presentar

para la presente legislatura planificación orientativa porque

condicionada por los recursos económicos disponibles y es en esa ley de presupuestos donde se recogen los objetivos las acciones e indicadores de cada uno de los departamentos organismos

esta es una forma habitual y normal de planificar la actividad de la administración está técnica estaba perfectamente asentada en nuestra comunidad esta metodología

que están recogidas en el correspondiente programa de legislatura al que he hecho referencia someramente anteriormente la ley de presupuestos

anual insisto planificación que se realiza evidentemente y como no puede ser de otro modo atendiendo las necesidades del sistema y sobre todo atendiendo a las necesidades de las personas usuarios de nuestro sistema de salud

tienen como fin último su bienestar porque de poco sirve

presupuestario que es necesario valorar y cuantificar según la concreta coyuntura económica y además la legislación presupuestaria y la planificación

y ese seguimiento y ejecución presupuestaria son las que marcan la evaluación de lo comprometido pero no solo eso y es que como no podía ser de otro modo

información puntual vinculada tanto al seguimiento y la ejecución presupuestaria como a las demandas de información que se trasladan a los diferentes grupos parlamentarios cuando así lo solicitan

por si esta evaluación continua no fuera suficiente precisamente por este claro compromiso del gobierno vasco

evaluación hemos considerado adecuado plantear que el departamento de salud realice una evaluación de las inversiones

y en este punto quiero agradecer la disposición del grupo popular en facilitar el acuerdo

una enmienda de transacción que creemos más adecuada y ajustada a la realidad

dotado de las mejores infraestructuras instalaciones y equipos un modelo sostenible y equilibrado territorialmente y su firme compromiso porque continuar desarrollando un sistema sanitario

universal y de calidad un sistema al servicio y a disposición de todas las personas eskerrik asko eskerrik asko

por los cinco grupos políticos presentes en este parlamento y lograr un acuerdo necesario en el campo de las inversiones para potenciar fortalecer

en elkarrekin podemos con esa idea sin embargo las parlamentarias

partido nacionalista vasco laura garrido del partido popular

nos han presentado sus opiniones alrededor de un plan de inversiones que satisfaga las necesidades de la población vasca quién está en contra de esto y hemos visto que no ha sido posible el acuerdo entre los cinco grupos políticos y no ha sido posible el acuerdo porque hay un aspecto que es tomar decisiones en clave democrática que no se ha contemplado ni por parte del partido nacionalista vasco ni de por parte del partido socialista ni por parte del partido popular era una propuesta sencilla

sus dirigentes y el departamento de salud tienen que ir acostumbrándose a trabajar en claves de transversal democrática

no solamente en el plan de inversiones y de infraestructuras sino en un conjunto de decisiones que tiene que ver también con recursos humanos tienen que ver también con lo que llamamos la democratización de la estructura en este caso es por lo que elkarrekin podemos no va a votar si viene al caso

sino que va a apoyar la enmienda de eh bildu si fuese el caso porque contiene estos elementos elementos de escuchar acordar

no solamente las del propio partido a los sindicatos a las asociaciones ciudadanas implicadas en los temas que tenemos que ver para diseñar un plan de inversiones para diseñar un plan de tecnologías dicho esto

voy a plantear algunos criterios que están a la literatura internacional en los grupos políticos en las sociedades científicas para ver cómo evaluar y cómo hacer un plan de inversiones que responda

a lo que los tiempos nos exigen

por parte de nuestro gobierno para evaluar el plan de inversiones realizado y para diseñar el plan de inversiones y de equipamientos en marcha

en primer lugar tener en cuenta las desigualdades en salud entre la ciudadanía

en la población vasca tal como marca el plan de salud de euskadi como bien dice la parlamentaria natalia rojo aprobado por unanimidad hasta el dos mil veinte y con un presupuesto ridículo de cuarenta mil euros que hemos intentado

para el plan de salud o para las estrategias de promoción o para las unidades de vigilancia epidemiológica

no ha sido posible se han rechazado todas las propuestas que hemos hecho no sé como el plan de salud va a regir

sin o con apenas presupuesto y sin embargo las desigualdades de salud son importantes como criterio para marcar las políticas de inversiones y para marcar las políticas de equipamiento y tecnología no todo el mundo enferma igual en euskadi

sí médicamente pero no socialmente no todos los grupos sociales mueren y enferman o tienen invalideces igual nos interesa saber a los políticos a los legisladores a los planificadores a los dirigentes de osakidetza

dónde se enferma más qué grupos sociales tienen peores condiciones de salud más diabetes más ictus más obesidad más cáncer de pulmón

más insuficiencia respiratoria más cardiopatías más y dónde

en vez del código genético es rigurosamente cierto en este momento la determinación social de la salud es fundamental y las desigualdades sociales en nuestro pueblo marcan las desigualdades sociales de salud

deben ser orientados prioritariamente las inversiones los recursos y las tecnologías y hay información abundante en la página web del departamento de salud y en la página web de las unidades de vigilancia epidemiológica para indicarnos se enferma más y de qué la segunda cuestión que queremos plantear como criterio de evaluación y de diseño del plan de inversiones es tener en cuenta la dinámica poblacional cuántos somos en euskadi se está creciendo

que hemos disminuido en trece mil vascos y vascas en el último año

o hay sitios que se crece de una manera o de otra efectivamente la población de euskadi crece de forma desigual y crece de forma desigual y en sitios desiguales la población inmigrante cinco o seis por ciento lo sabemos sabemos los promedios dónde se concentra en casco viejo en san francisco en la dónde se concentra en pasajes

se ponen en veinte por ciento de la población residente en pasajes los senegaleses en ondarroa en bermeo en mi opinión

que sabemos qué es aproximadamente doce por ciento de la población inmigrante que convive con nosotros y con nosotras

y organizar sistemas de atención integrales e integrados

conocemos los promedios pero poco las diferencias tenemos barrios envejecidos

como basauri como barrios de sestao barakaldo trapagaran barrios que están por encima del veintisiete por ciento de mayores de sesenta y cinco años otros

esa dinámica poblacional es esencial que se conozca y que se tenga en cuenta por nuestros epidemiólogos y epidemiólogas y por la gente que diseña las inversiones

tecnologías la tercera el tercer criterio que planteamos es tener en cuenta los planes de construcción de vivienda y de transporte

me pasas el plan de vivienda por favor el plan de vivienda

pero el plan de vivienda por municipio y anual o de todas las legislatura primero de por municipio y anual y luego de todas gracias iñaki de nada jon te lo mando enseguida

intersectorialidad de las políticas de salud los planes de vivienda anuales

qué perspectiva tiene se planifican y los recursos de tecnología como los recursos de acceso a la vivienda como los recursos de comunicación y transportes se planifican y se interinforman entre la distinta gente que toma decisiones en nuestro gobierno si no habrá chapuzas

un plan de legislatura para las infraestructuras de salud la cuarta y último criterio y voy acabando es que las tecnologías sean puesto efectivas para que los procesos de

las multinacionales de tecnología médica someten al servicio vasco de salud a múltiples y variadas presiones

sobre dirigentes jefes clínicos médicos políticos también actúan sobre los medios de comunicación desarrollando culturas de consumo de tecnología en el sector privado

los equipamientos y tecnología deben funcionar a tiempo completo mañana y tarde hay algunos que así lo hacen como los aceleradores lineales para tratamiento de cáncer pero hay otros que cierran a las quince cero en los tres territorios las técnicas y procedimientos que se ofrecen a la población

crean demandas de forma indiscriminada luego necesitamos que cada tecnología cada tac cada equipo de resonancia cada ecografía cada ecocardiografía cada

utilización racional de nuestra tecnología los periodos de amortización de la tecnología acabo ahora presidenta

no se puede permitir no utilizar racionalmente los equipos técnicos por último

cada equipo y esta es la idea central que quiero trasmitir tecnológico cada infraestructura cada centro debe utilizarse con quien lo necesite

hay que evaluarlo periódicamente de forma democrática necesitamos evidencia científica y criterios de necesidad en nuestra opinión

y para desarrollar el plan de infraestructuras y equipamiento que se solicitan más democracia en la toma de decisiones

no le entiendo cuando habla de más democracia en la toma de decisiones no sé si no le parece suficiente que hoy los representantes legítimos

de votar dicho acuerdo parece ser que finalmente su posición va a ser

no por el acuerdo y el contenido del acuerdo en sí sino más bien arrastrado por la posición que la señora blanco ha tenido en esta

uria que ustedes no han presentado una enmienda a la totalidad entiendo que con lo que

y una planificación por lo tanto creo que sinceramente usted ha intentado vestir su voto

iniciativa de eh bildu pero ya digo que inicialmente ustedes no habían presentado ninguna aportación a la propuesta inicial

usted hablaba de igualdad yo en mi primera intervención he hablado de equidad precisamente planificar

en equidad a los servicios sanitarios creo señora blanco efectivamente no se recoge una reivindicación suya concreta que es el tema de la participación

agentes sociales pero creo que el acuerdo sí recoge fundamentalmente también lo que usted hoy ha planteado en esta tribuna y lo que usted planteaba también en su propuesta que se

a lo que usted además ha hecho hincapié aquí en su exposición y por otra parte que se haga una planificación de los recursos sanitarios por lo tanto yo creo que las cuestiones fundamentales que usted recogía en su enmienda de totalidad de alguna forma están recogidas en este

cuestión yo creo que la posición del partido popular en materia sanitaria siempre ha sido clara coherente nosotros señora rojo

si usted la quiere denominar tercera infraestructura de crónicos específicamente para la ciudad de vitoria porque

características para dar cobertura a las necesidades de hospitalización que tienen los enfermos crónicos la pasada legislatura en el plan inicial la pasada no la noveno legislatura en la que gobernó patxi lópez

se habló de dar o cubrir las necesidades de hospitalización de los enfermos crónicos en el hospital santiago

se elaboró un plan funcional concreto esta legislatura esa propuesta inicial

están de acuerdo por lo tanto creo que aquí el que ha modificado su posición más bien ha sido el partido socialista que reivindicaba en la legislatura anterior

centro específico para los enfermos crónicos en vitoria nosotros

defendiendo y vamos a seguir reclamando obviamente que se dé satisfacción a esa necesidad histórica que tenemos con los enfermos crónicos pluripatológicos los enfermos subagudos en la ciudad de vitoria que se tienen que todavía desplazar a leza y por finalizar a la portavoz del

que efectivamente el consejero desgranó aquí las líneas generales de su departamento que a su vez eran las que se contenían en el programa de gobierno esos compromisos pero también le tengo que decir que él mismo hablaba de que los compromisos no eran tan compromisos cerrados tuviera más presupuesto para ejecutar las inversiones previstas a un ritmo o acelerar el ritmo de ejecución de dichas inversiones incluso ir más allá

popular con las enmiendas que hemos presentado incrementando cuantías ya previstas para inversiones sanitarias en los tres territorios y poniendo más partidas específicas para nueva inversiones cuando habla usted de planificación orientativa

disponibilidad presupuestaria y también condicionará futuros acuerdo que pueda haber en esta cámara en la que podamos llegar a acuerdos en relación

en el ámbito sanitario finalmente por acabar señora presidenta decir que satisfechos con el acuerdo hemos planteado

estas dos semanas que se han aprobado una es la de que el gobierno haga una planificación de las inversiones sanitarias con una evaluación de lo ejecutado en la anterior legislatura y por otra parte

en relación a que el gobierno elabore un plan de reducción de listas de espera no fue en ese caso posible el acuerdo con el gobierno porque el gobierno tenía una posición más inmovilista y de alguna forma pues no pudo ser

el gobierno con su propuesta desvirtuaba el acuerdo inicial por lo tanto

al gobierno deberes que es lo que hace el partido popular a través de sus iniciativas besterik

la señora otalora nos decía que el lehendakari había dado las explicaciones pertinentes en cuanto a la inversión en ese programa de gobierno pero yo me voy a centrar en otras dos comparecencias precisamente del consejero de salud en esta

en una primera comisión cuando vino a presentarnos sus líneas estratégicas las del departamento de sesenta y dos páginas de transcripción una solo se dedica a inversiones

de treinta y seis páginas una solo se dedica a inversiones además parecía repasando las transcripciones que no le gustaba mucho que los demás grupos

por tanto de noventa y ocho páginas de transcripción dos folios para ustedes entiendo que esa es la participación de los grupos que se limita a eso

pensar cómo va a ser la carretera que va a unir a los usuarios y usuarias con ese centro hospitalario

seguramente también será pensar en un centro de alta resolución novedoso y necesario con ciertos servicios y terminar siendo un hospital comarcal que no cumple las expectativas iniciales ni por asomo o inaugurar un centro de salud de prisa y corriendo bonito por fuera y apuntalado y con escombros por dentro o retrasar una y otra vez

y utilizar y vender su necesidad en una campaña electoral o pensar en un centro de salud al que se accede mediante zonas peatonales y pasos elevados

para un transporte sanitario urgente o inaugurar un hospital de día aquí al lado y ese mismo día el techo de ese hospital de día vence o hacer resonancias magnéticas

seguramente para ustedes eso es una buena planificación en inversiones pero claro es que como la culpa de todo esto la tiene eh bildu verdad señora rojo la tiene eh bildu siempre tenemos la culpa de todo son nuestros alcaldes alcaldesas zinegotzis y junteros y junteras los que están frenando

los trabajadores que estuvieron haciendo el techo del hospital de día en el hua era también votantes de eh bildu lo hicieron aposta para que se cayese

comentar yo creo que la señora otalora lo ha entendido muy bien ha llegado un momento en que se ha alejado de la negociación porque ha visto

lo que no pueden hacer señora garrido es intentar vendernos algo que no es porque me dice usted que esta enmienda transaccional recoge básicamente lo que nosotros y nosotras decíamos en la enmienda de la totalidad y no es cierto

de valoración de estos cuatro últimos años tener en cuenta esa valoración para que de una manera participativa

teniendo en cuenta agentes sociales sindicales a grupos políticos no tiene nada que ver con lo que aquí se ha aprobado aquí lo que se ha aprobado es

que entiendo que no conllevará a nada más y una planificación orientativa de acuerdo al programa de gobierno y a los presupuestos de dos mil diecisiete sí

escuchando las bondades de un acuerdo presupuestario

hasta ahí que será muy interesante pero eso es lo que ustedes han firmado y usted lo ha explicado muy bien en su primera intervención porque creo que decía textualmente

las aportaciones del partido popular a los presupuestos y se trata

de eso se va a vender la gestión de los cuatro últimos años y se va a presentar una planificación para contar cuáles han sido sus aportaciones al presupuesto se acabó los demás no entramos y como no entramos pues evidentemente no vamos a apoyar esta enmienda transaccional y termino

porque siempre siempre hemos pensado que esos acuerdos eran buenos para la ciudadanía con el grupo socialista también

en ninguna negociación la pasada legislatura la señora garrido ha tenido mucho más interés en llegar a un acuerdo conmigo que usted y la legislatura pasada la señora garrido en ninguna de las negociaciones tuvo más interés en llegar a un acuerdo conmigo que la señora blanca roncal dígame usted quién se mantiene en su posición y quién se ha movido porque no ha hablado conmigo para nada en esta negociación ahora me dirá que ya he tenido una interlocutora que ha sido seguramente la señora representante del pnv que es la que representa al gobierno y usted

pero le recuerdo que en su primer turno no sé cuántas veces lo ha nombrado

bajo el punto de vista del grupo socialista señor bengoa grupo socialista grupo socialista y en esta ocasión la señora del grupo socialista conmigo no ha hablado dígame usted quién se ha mantenido en su posición y quien se ha movido eskerrik asko

mire señora blanco es que me parece absurdo entrar en este discurso infantilista de quién llama a quién

pues mire me parece absurdo pero es que usted llega a la absurdez que luego continuaré con sus absurdeces si existe la palabra en la rae que ya no lo sé yo no he hablado con usted y usted conmigo digo pregunto o es usted mucho más importante que el grupo socialista para que tenga que llamarle yo a usted yo

colectivo de los portavoces de salud enviado por usted en el que nos decía lo que opinaba de una propuesta de es que me parece absurdo esta hablando de esto en la tribuna

no eso es llamar a la señora rojo en este caso digo es que usted viene aquí a contar que si yo no le he llamado mire es que yo no estoy aquí ni para hacer amigos ni para hablar ni para contestar ni para nada estoy aquí para cumplir mi trabajo

igual es que nosotros sí es que el departamento de salud lo dirige y lo gestiona el señor darpón del partido nacionalista vasco

para hablar de la economía circular digo para que entiendan los esquemas de negociación porque yo yo hablo con la señora del partido nacionalista vasco sobre en qué estamos de acuerdo y luego hablamos con la oposición que son ustedes señora blanco

en esta tribuna en esta legislatura en el parlamento vasco ha bajado un poquito el nivel un poquito de lo que se hablaba antes y de los que se habla ahora

ni de parlamentarismo ni de negociación ni dónde estamos unos y dónde están otros

medir la importancia de las cosas por las hojas que ocupan en un documento

y así gastemos un poquito más de hojas porque mire señora blanco las inversiones se miden en la cantidad presupuestaria que un gobierno aporta a algo y esa hoja que para usted es tan nimia estaba dividida en tres columnas fíjese si me preparo los temas

tres columnas cada una por provincia en el que explicaba el montante de millónes de euros que el gobierno vasco iba a invertir en el departamento de salud por cierto

acordada vale menos porque está en una hoja digo pregunto o es que hay que poner los millónes de euros

diga que no quiere acordar con los partidos del gobierno diga que no está de acuerdo con el contenido de la enmienda diga que van a hacer el no

porque es la estrategia elegida por bildu en este momento pero utilizar que una parlamentaria no le llama para decir

que es que formamos parte de un gobierno de coalición o todavía no lo hemos pillado que las

y la lealtad forma que cuando tú formas parte de un gobierno negocias y pactas

y luego intentas llegar a acuerdos políticos con el resto señor uria acuerdos en clave democrática porque tan democrático es lo que propone usted

clave democrática entre demócratas de partidos democráticos entonces no le voy a permitir que diga

no son en clave democrática diga que no son en clave de podemos o la clave democrática de podemos es en círculos para volver a los círculos de antes o en asambleas

que no que no le gusta a usted lo que decidimos perfecto voten en contra pero no digan que no tienen democracia o que no están hechas en clave democrática porque no se lo voy a permitir ni a usted ni a nadie lecciones de democracia no lo acepto

igualdad en los servicios sanitarios que debe recibir la ciudadanía vasca por supuesto estoy de acuerdo que hay que escuchar que hay que acordar que hay que conocer claro para acordar hay que escuchar y para acordar hay que conocer hay que hacerlo todo

que venimos a hacer otra cosa venimos a una oposición yo entiendo que ustedes digan nos gustaría tener una evaluación de lo que este gobierno plantea en sanidad de lo que se ha hecho antes un diagnóstico

y una planificación y yo le he dicho les he dicho a los dos grupos que van a votar en contra que yo hablo de planificación de servicios

porque es a eso a lo que estamos y entonces el partido socialista nada ha cambiado el partido socialista era oposición y somos gobierno y hay una cosa que se llama lealtad

por qué porque no saben llegar a acuerdos y a la historia me remito

y quienes han estado mirando manifestándose fuera trayendo camisetas y votando todo en contra eskerrik asko rojo andrea

que la decisión concreta de cada uno de los proyectos que se van a poner en marcha anualmente

exceden al ámbito estrictamente sanitario distribución equilibrada de recursos disponibilidad de ubicaciones adecuación de instalaciones

en este como en otros ámbitos en todo caso hemos acordado con el grupo socialista y el grupo popular que el departamento de salud haga una planificación orientativa

pero bueno planificación que debe de hacerse desde la responsabilidad y desde el realismo que nos proporcionan los recursos económicos existentes veamos hasta dónde podemos llegar con los recursos que disponemos en este sentido consideramos que el gobierno ha demostrado año a año un firme compromiso

tecnología acordes a las necesidades asistenciales de nuestra ciudadanía dotando a los presupuestos del departamento de salud de una importante dotación económica a tales efectos

con inversión adecuada a todos ellos atendiendo a las necesidades prevalentes señora blanco señor uria a la hora de analizar las necesidades se tiene también en cuenta

que son quienes conocen estas necesidades de primera mano y en su caso de la ciudadanía no entendemos en cambio el planteamiento que

blanco en el sentido de que se deba recabar la opinión de los sindicatos cuyo ámbito de actuación entendemos que se debe de restringir a la defensa de los intereses de las y los trabajadores evidentemente al ámbito de la negociación colectiva

como bien ha indicado también usted hemos intentado el acercamiento

señora garrido sin perjuicio del acuerdo al que hemos llegado déjeme que le diga una cosa en todos los territorios se hace un importante esfuerzo inversor en todos en álava también por supuesto no tiene más que hacer un análisis una revisión de las inversiones que se realizaron la legislatura pasada

señor uria me quedo con los conceptos

sanitario vasco los prefiero a los que usted califica de falta de democracia y de supuestas desigualdades lamento que no se sume al acuerdo

en invertir en un sistema sanitario público que sea sostenible el gobierno tiene un claro compromiso por una sanidad pública de calidad

sin duda este esfuerzo inversor siempre merece la pena en aras a la preservación y mantenimiento de nuestro sistema sanitario

y hay que seguir trabajando para que se mantenga así en todo caso creemos que

lo que no quiere decir que no haya margen de mejora siempre la hay como en cualquier ámbito de la vida en eso estamos tanto el gobierno como los grupos que lo apoyamos

público universal y de calidad eskerrik asko eskerrik asko otalora andrea eta amaitzeko elkarrekin podemos taldearen ordezkaria